eta euskal udal autonomia printzipioa bermatuko du en esta materia recientemente debatida en esta cámara nos gustaría hacer tres breves referencias que consideramos relevantes una al pasado

respecto al pasado es de justicia recordar nuevamente que la aprobación de esta ley

lo más amplio posible para las instituciones locales vascas fue posible

de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local en las cortes generales donde defendió e hizo valer nuestros derechos históricos y nuestra singularidad foral

en cuanto al presente la recién aprobada ley de instituciones locales de euskadi constituye junto con el estatuto de autonomía de gernika y la denominada ley de territorios históricos

un modelo vasco propio de autonomía local y evitando así la restricción de la autonomía municipal establecida por la legislación básica estatal

tras su publicación en el boletín oficial del país vasco ha entrado en vigor con fecha quince de abril es decir hace tres semanas y es aquí donde

el difícil equilibrio entre los tres niveles del sistema institucional vasco gobierno vasco diputaciones forales y ayuntamientos

donde como recordarán entre otros temas se establecían importantes mecanismos de cooperación y coordinación interinstitucional hace unos días

el lehendakari decía que ahora queda desarrollar la ley un trabajo e intenso que corresponde a todos los niveles institucionales especialmente al nivel local y solicitaba también lealtad institucional en ese trabajo gure galdera beraz

hor kokatu behar dugu gure ahalegin eta esfortzu guztia con independencia por tanto de la posición que unos y otros hayan podido mantener en torno al proyecto mientras era proyecto a lo largo de su debate en esta cámara e incluso antes del mismo

en este momento a trabajar de manera coordinada en clave de colaboración para procurar una aplicación un cumplimiento cabal y armonioso de la normal para ello hay dos líneas de actuación

es necesario promover la difusión más amplia posible de la ley entre las instituciones a las que afecta

fundamentalmente cargos públicos y empleados públicos de las administraciones locales que están llamadas a adquirir un protagonismo especial en el proceso de cumplimiento y de ejecución de la ley

organizado ya varios seminarios y jornadas llamadas a

y con otras administraciones forales y municipales a través del instituto vasco de administración pública usted ha hecho referencia efectivamente a una jornada institucional que tuvo lugar en bilbao a la que asistieron más que cuatrocientos cincuenta personas pero hemos llevado a cabo también otros actos

y hay programados otros actos durante los meses de mayo y junio promover esta difusión a través del instituto vasco de administración pública entre el conjunto de la administración local pero con independencia de este esfuerzo de difusión que es obligado y estamos llevando a cabo

a todas las instituciones que conforman el mapa institucional de euskadi todas por tanto están llamadas a llevar a cabo

hay cuatro previsiones concretas haciendo llamamientos al desarrollo reglamentario de la ley en los artículos once quince ochenta

hay dos mandatos concretos a los municipios para que en dos años elaboren sus portales de transparencia y en cuatro años elaboren sus cartas de servicios hay mandatos dirigidos a eudel para que en dos meses designe a sus representantes en el consejo vasco de finanzas

de la comisión mixta que va a atender va a afrontar la problemática de la financiación de los euskaltegis hay un mandato al consejo vasco de finanzas públicas también

y financiación al que se refiere la disposición transitoria séptima a los órganos forales de los territorios históricos se les encomienda la labor la tarea de poner en marcha los mecanismos de participación de las administraciones locales en el proceso de elaboración de las normas forales previsto en el artículo noventa y dos hay insisto mandatos dirigidos a todas las instituciones el mapa institucional de la comunidad autónoma de euskadi estamos en el empeño estamos trabajando de la manera más coordinada posible para que una ley que ha sido aprobado por la cámara con una amplia mayoría cuente

y cuente con un consenso pleno y absoluto en el ámbito de la administración local

leímos ayer en prensa que el lehendakari se negaba a reunirse con ela con una actitud que en nuestra opinión no puede ser la de un lehendakari un lehendakari tiene que estar dispuesto a sentarse

y en nuestro caso lo que pedimos lo que preguntamos también al lehendakari es sin necesidad de ninguna prepotencia ni ninguna arrogancia ni ninguna soberbia pero si no sería necesario un poquito más de firmeza de esa firmeza exhibida

al sindicato mayoritario de la comunidad autónoma vasca un poquito de esa firmeza con respecto a quien no permite materializar las decisiones que tomamos

con respecto a quien a día día está vaciando nuestro marco

impidiendo así que podamos desarrollar en su plenitud las políticas sociales y económicas que querríamos para el bien de nuestros ciudadanos y ciudadanas

para ser más concretos y más directos quizás quisiéramos saber porque en la ponencia de autogobierno estamos con el partido nacionalista vasco entre otros partidos y estamos dispuestos ese trabajo y esa dinámica de colaboración por supuesto pero quisiéramos saber cuál es

de este gobierno para defender nuestras instituciones y sus propias decisiones

a hacerlo o si su única estrategia es esperar esperar sentados

deciden cambiar de gobierno y esa sería nuestra única estrategia

o si por contra nosotros y nosotras vamos a hacer algo por lo nuestro para defender lo nuestro e incluso para ampliar nuestros márgenes de decisión

remitimos los informes solicitados por la ponencia de autogobierno en los que afirmábamos

políticas recentralizadoras de carácter estructural de intensidad desconocida hasta el momento ante esta situación defiendo una estrategia de respuesta una estrategia compartida

que tiene pendiente acordar un diagnóstico compartido del autogobierno y sentar las bases para su actualización y sobre esta base

que permita actualizar el autogobierno un acuerdo que sea ratificado y respetado un pacto que introduzca garantías de cumplimiento efectivo la historia nos ofrece la fórmula de los derechos históricos de los territorios forales también la garantía de la bilateralidad a través del pase foral o sobrecarta he planteado

articulando jurídicamente el aplazamiento de las normas dictadas por el estado hasta que no se negocie su interpretación y aplicación efectiva con las instituciones vascas el pase foral es la vía que permite actualizar el pasado para compartir el futuro para compartir el futuro es la garantía de una convivencia equilibrada

a iniciativa socialista decidimos que no bastaba con seguir reclamando que actuara europa y que actuará el gobierno de españa que también

de más recordar que tenemos competencias exclusivas en industria

a quienes en estos momentos ven amenazado su futuro en especial en determinadas comarcas con asentamientos de grandes empresas que amenazan con desmantelar

mandamos ese mensaje a los trabajadores directos y también a los indirectos y al conjunto de esas poblaciones que es lo que expresamente los socialistas quisimos tener en cuenta porque no se olviden que es la negociaciones de los ere no se tienen en cuenta a las industrias auxiliares

a los comerciantes y hosteleros que sufren desde el minuto cero las paradas de plantas dos días después esos trabajadores salieron a la calle en bilbao con esta misma reclamación una verdadera política industrial que echan en falta

y exigió nuestra respuesta lehendakari tiene usted una reclamación de miles de personas tiene usted un mandato y un respaldo unánime de este parlamento por eso le pregunto ante este clamor si tiene un plan de verdad y si ese plan

para favorecer estrategias de viabilidad de empresas en riesgo con el fin de garantizar

aspaldian hasi ginelako kontsideratuz energiaren prezioa gai latz bat zela y tal como además ayer tuvimos ocasión de analizar en un

además de iniciativas llevadas a cabo en europa que realmente son importantes de cara

desde el mismo enero esos son en cuanto a iniciativas que se han llevado a cabo en dos ámbitos que no son directamente competencia nuestra es cierto pero donde

en todos y cada uno de los ámbitos en los que ha sido posible en cuanto a lo que hace referencia a nuestras propias herramientas como usted decía en cuanto a las plantas de acb

evidentemente en lo que hace referencia a las dos plantas nuestro plan es el de siempre el que hemos actuado siempre en

de la mano de los trabajadores y de la mano de la empresa como gobierno nunca podemos sustituir a la iniciativa privada tenemos que trabajar de la mano y hemos planteado como usted sabe y la última de las opciones fue precisamente después de la comparecencia del comité de empresa de zumarraga aquí en este parlamento hemos planteado a la llevar a cabo de la mano con las instituciones vascas un plan de viabilidad que nos permita analizar conjuntamente inversiones a llevar a cabo planes de formación

social y económicamente las comarcas próximamente tenemos una reunión con la dirección de la empresa y esperamos poder trabajar este plan de viabilidad insisto de la mano de la empresa y de la mano de los trabajadores con un acuerdo pleno tanto en la mesa del acero constituida como con cada uno de los comités
en acb en un caso y en zumarraga en el otro eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea azkue jauna zurea da hitza

nos tienen ustedes detrás en todo lo que se necesite ante las crisis

y ante todos los intentos que debamos de hacer con respecto a intentar no cerrar o que no cierre ninguna planta de vez en cuando incluso delante en cualquier caso

algo que sé señora consejera que no le gusta que se discuta si tenemos política

se lo escuche hace pocos días en el forum europa y entiendo que no le guste pero las políticas industriales que valen por lo menos en nuestro país que siempre ha sido industrial son las que sean capaces de prevenir

de este tipo sean capaces de prevenir independientemente las crisis que también no vienen por sí solas sino vienen normalmente con capacidad de análisis con lo que también hay que adoptar medidas a eso venimos los socialistas hoy a decirles mire tenemos presupuestos tenemos cantidad de programas pero no son válidos en estos momentos para dar solución a este tipo de crisis cambien por eso pedíamos la involucración que estuviese involucrado el lehendakari

los presupuestos que haya posibiliten que se dé una respuesta distinta a la actual crisis no hay crisis iguales y las respuestas tienen que ser diferentes por eso señora le decía

adecuada y debemos de tenerla no puede ser legado de este gobierno que no la haya eskerrik asko eskerrik asko azkue jauna erantzuteko tapia andrea zurea da hitza

eskerrik asko presidente andrea azkue jauna lo que usted me escuchaba el pasado miércoles es que decía no que no me guste que me digan

que nos gustarán unas medidas o no nos gustaran otras pero que política industrial en este país existe y acepto las críticas evidentemente siempre y cuando sean constructivas por tanto aceptadas pero siempre a lo largo de estos años de estos tres años y medio de legislatura con el lehendakari al frente evidentemente soy yo la responsable pero es él el que preside el consejo de gobierno como no puede ser de otra manera ponemos en marcha

soluciones individualizadas porque como usted dice no hay soluciones iguales en este caso insisto siendo esta crisis del acero global

yo creo que nos enfrentamos a unas semanas críticas en este momento para las plantas de zumarraga y de acb prudencia diario de la mano de los trabajadores y de la mano de la empresa eso es lo que tenemos que hacer analizar detalladamente las posibilidades analizar detalladamente qué podemos hacer

pero siempre con la implicación de las empresas de forma discreta y de forma de un análisis evidentemente adaptado a cada una de las necesidades siempre

bere porrota onartu ondoren sí señor lehendakari parece mentira que le tengamos que hacer esta pregunta

y sobre una materia en la que ustedes tienen competencias y propias desde luego aquí no hay fantasmas recentralizadores con un ingente presupuesto con

con un número de cobros indebidos que alcanza la cifra de ciento veintiocho

apenas se han recuperado un trece por ciento con una tasa de intermediación de un tres coma trece por ciento que no va a cumplir el objetivo que ustedes se fijaron del cinco por ciento con un sistema

reconoce como búsqueda de empleo tal y como constató su viceconsejero un miembro de su propio gobierno por eso le preguntamos qué criterios

lanbide una vez que un miembro de su propio gobierno ha constatado su fracaso y ser así de utilidad a la sociedad vasca eskerrik asko

no ha constatado que lanbide haya fracasado se lo digo sinceramente usted está haciendo referencia a unas declaraciones que resultaron no ser acertadas y que el propio viceconsejero

también se ha disculpado ante los trabajadores mediante carta que ha sido recibida con agrado sailburuordearen asmoa lanbidek etorkizun laburrean zeukan erronkez

respeto absoluto al consejero pero vemos una vez más que este lehendakari es incapaz de dar la cara

yo voy a poner hoy voz a los miles de ciudadanos vascos que ven como su gobierno el que usted preside

y es incapaz de poner el instrumento fundamental que tenemos las políticas activas de empleo al servicio del principal problema que tenemos que es el empleo su ineficaz

de su inacción como gobierno han estado a verlas venir

de agarrar el toro por los cuernos como hemos visto hoy aquí cuando usted no sale ni a esta

pasividad absoluta y la nula gestión y la falta de resultados en esta materia

era el eslogan de su gobierno en el principal problema que tienen los vascos señor lehendakari su fracaso personal ahora seguramente el consejero en su respuesta se sacará algo de la chistera algún anuncio propagandístico

en un experto pero ya no le vale señor lehendakari no le vale porque las cifras son tan contundentes las cifras de su gestión

que continuamente le están dejando en evidencia y no le vale cuando hay miembros de su gobierno

lo que todo el mundo piensa la inutilidad de lanbide ya señor lehendakari no engaña a nadie y qué va a hacer señor lehendakari para dar la vuelta a esta situación y poner al servicio de una vez por todas al servicio de todos los vascos

en donde tenemos competencias plenas como es las políticas activas de empleo y ponerlas de una vez por todas al servicio de la ciudadanía vasca

permítanme que les diga señor lehendakari señor consejero que nuestra confianza en lo que nos vayan a anunciar ahora es nula

oídos sordos a todas las propuestas que este partido ha puesto encima de la mesa en positivo todas las propuestas y las cosas que hemos tenido que oír y ver y en segundo lugar porque ya ustedes están en tiempo de descuento

eskerrik asko mahaiburu andrea señora garrido nos encontramos ante unas declaraciones desacertadas ante las que ya se han pedido disculpas y usted hace

que ha avanzado significativamente durante esta legislatura significativamente quisiera hacer hincapié en que la intermediación es el último eslabón de una cadena que empieza en el conocimiento

conocer capacidades y necesidades que tiene dotarle de la formación necesaria para desarrollar nuevas capacidades que le ayuden en posicionarse mejor en la búsqueda de empleo

puedan ofrecer a las empresas lo que estas necesitan y logren el mejor empleo posible solo le voy a trasladar unos cuantos ejemplos el número de diagnósticos personalizados por parte

incrementado en un ciento ochenta por ciento desde el dos mil trece en un ciento ochenta por ciento el número de itinerarios personalizados lo hemos incrementado en un setenta por ciento se han realizado más de dos mil acciones formativas en las que han participado más de veinticinco mil personas

tras esta formación y este es un dato importante más de un cuarenta por ciento de las personas han conseguido trabajo antes de seis meses

empresas ofertantes de empleo en dos mil trece a casi seis mil señora garrido garrido andrea zuen alderdiak

y no le parece señora garrido que puede usted mirar a todas las comunidades del partido popular o de otras regidas por otros partidos que están en españa para ver cuáles son sus índices de intermediación para ver cuáles son los logros de su gestión

de que hagamos comparaciones y de que no pongamos lanbide al pie de los caballos cuando lanbide ha hecho mejoras muy significativas a lo largo de toda

esta legislatura sabemos que tenemos cosas por hacer sabemos que tenemos cosas pendientes pero no eche atrás usted los logros que hemos conseguido eskerrik asko eskerrik asko

señor lehendakari señor consejero de empleo efectivamente ustedes han explicado recientemente

cuáles han sido los logros de su gobierno en lo que se refiere a lanbide y al empleo su viceconsejero de empleo dijo hace unos días

a lanbide para buscar un empleo porque poco se encuentra resumen del trabajo realizado por parte de este gobierno en relación a lanbide

atrás no demasiados meses dijo que las empresas no acuden a lanbide tienen sus propios mecanismos de contratación y pasan de lanbide

su viceconsejero hace unos días dijo lo que dijo que a sus hijos ni se les pasaba por la cabeza acudir a lanbide para buscar un empleo y usted hace escasos meses dijo también lo que dijo en fin parece

servicio vasco de empleo pongan en duda la utilidad de este organismo y reiteren que no es un instrumento eficaz

ni para los trabajadores o para las personas que quieren buscar un empleo pero es que esto lo dicen los propios miembros del gobierno no es que hayan llegado

muchas cosas por hacer y efectivamente se pongan a ello sino que

un trabajo que no han realizado por eso la pregunta evidentemente es directa al lehendakari sigue confiando en su equipo sigue confiando en los responsables que han realizado estas declaraciones

y otra cosa más señor consejero usted ha dicho recientemente que el viceconsejero se ha disculpado pero por qué se ha disculpado el señor viceconsejero por decir lo que tenía que haber callado o por no haber hecho correctamente su trabajo durante estos años esto es importante es decir uno puede disculparse porque efectivamente reconoce

o porque en fin en un momento dijo aquello que no tenía que haber dicho nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on berriro estimado señor maneiro también estimado el departamento que dirijo está capacitado para realizar de manera satisfactoria con responsabilidad con ilusión y con trabajo

tengo la total confianza en todas las personas y en cada uno de ellos no solo confío en los cargos también confío en todas las personas que trabajan

voy a volver a recordar y no será la última vez en la sesión de hoy que las declaraciones a las que hace referencia no fueron acertadas

y vuelvo a reiterar y nos consta que fue recibida con agradecimiento y cercanía

somos personas que trabajamos para un gobierno que trabaja para las personas con la mejor de las intenciones y desde el convencimiento de que lo que hacemos sirve

la mejor euskadi que seamos capaces esto no es estar desazonado como usted me dijo ayer es hacer prevalecer el principio de realidad

los adultos al menos los adultos responsables trabajamos en esa esfera no dejamos atrás los deseos los mantenemos y los anhelamos pero sabemos que no siempre son posibles

gracias presidenta estimado y querido señor consejero no me ha respondido a una de las preguntas
por qué pidió disculpas el viceconsejero si por decir lo que tenía que haber callado o por no haber cumplido

dijo que sus hijos no irían en ningún caso a lanbide porque poco trabajo se encuentra allí es decir está reconociendo que uno de los trabajos que tenía que haber realizado durante estos meses durante estos años no lo ha cumplido

esta persona tiene que dimitir señor lehendakari es evidente que tiene que dimitir reconoce años atrás que uno de sus principales trabajos que tenía que haber realizado no lo ha hecho y que sus hijos como consecuencia de ese trabajo

nunca se apuntarían a lanbide para buscar un empleo la lógica es aplastante no ha realizado su tarea cuando una persona no realiza su tarea en un equipo de gobierno lo que tiene que hacer es dimitir lo que pasa es que en este caso concreto claro

públicamente lo dice públicamente ese es el error decirlo públicamente señor consejero se tenía que haber callado o el error es no haber realizado correctamente su tarea yo lo que creo es que tiene que dimitir por cierto ustedes no hacen más que pedir nuevas competencias tienen la competencia de lanbide y funciona como funciona

no pidan tantas competencias y ejerciten correctamente aquellas que ya tienen eskerrik asko maneiro jauna toña jauna zurea da hitza

señor maneiro no caiga en el recurso fácil de utilizar un error humano para echar tierra

favorece la inclusión y activa laboralmente a las personas en euskadi a través de lanbide se gestionan prestaciones que garantizan condiciones de vida para numerosas familias concretamente

a más de ciento veinte mil personas prestaciones además que tienen un impacto positivo

que contribuyen al proceso que ha cambiado de raíz la posición de euskadi en españa en materia de indicadores de acceso al empleo para estas personas lanbide sí sirve

como demandantes de empleo lo podrá hacer mejor lo hace como puede y cada vez mejor tal y como he indicado anteriormente realiza acciones formativas

y para estas también sirve siempre podrá servir más no se lo niego y en ello seguimos trabajando y lo seguiremos haciendo se están desarrollando junto con los ayuntamientos planes locales de empleo que atienden a las personas desempleadas más necesitadas y cubre además necesidades municipales los avances que se han dado en lanbide

casi mil sin la implicación de estas personas a las que tengo que agradecer como consejero el esfuerzo y el trabajo que han realizado durante esta legislatura

que ha avanzado significativamente durante esta legislatura y termino

que está usted realizando me recuerdan a un refrán que hemos utilizado esta semana en una campaña que se llama zas usteak erdia ustel

zurrumurruen aurkako sarea vamos a frenar los rumores que vienen podridos no quiera estigmatizar y desprestigiar un servicio joven pero que progresa

porque se equivocó y equivocarse es de humanos si usted no se ha equivocado nunca no pida disculpas no harán falta eskerrik asko

señor lehendakari la semana pasada el dirigente de

europeo y participó en diversos actos de propaganda política al objeto de blanquear su propia historia de relación

y de la propia banda terrorista básicamente para esto fue al parlamento para

de eta para contar una serie de mentiras durante su gira propagandística realizó varias afirmaciones que entendemos suponen un insulto y un menosprecio a las víctimas del terrorismo y al conjunto de la sociedad vasca que el parlamento vasco y usted mismo señor lehendakari como representantes de los ciudadanos vascos no debe no debemos dejar pasar así por actividades terroristas llegó a decir que todos hemos sido víctimas de un mismo conflicto y no haremos distinciones entre unos y otros porque el sufrimiento se mide con la misma escala

llegando a señalar algo que nosotros pensamos que es absolutamente inaceptable que todos los presos políticos deben salir a la calle y los deportados y refugiados deben regresar a casa cuando un conflicto ha terminado no se mantiene en prisión a quien ha participado en él

y pensamos que deben ser contundentemente rechazadas por usted mismo

parlamento de modo que dejemos claro que en españa no hay presos políticos y que los huidos de la justicia española no son refugiados políticos en un piso inferior de donde el expreso daba su charla

un grupo de demócratas de personas dignas se concentraba junto al salón de plenos para denunciar la presencia

de las víctimas del terrorismo un acto organizado por dos eurodiputadas maite pagazaurtundúa y teresa jiménez becerril quienes dieron otra vez

al enfrentar su verdad a las mentiras del expreso este parlamento vasco y el propio lehendakari deben alzar la voz en defensa de la dignidad

terrorista de eta un personaje con su trayectoria no puede ir por las instituciones europeas pretendiendo dar lecciones de democracia menospreciando o insultando a las víctimas del terrorismo o llamando presos políticos a los presos de eta sin que el lehendakari y este parlamento digan claramente

en esta interpelación que usted mismo y todos nosotros a continuación o casi todos digamos claramente que estas

usted tiene que decir que efectivamente no está dispuesta a aceptar

creo que usted mismo y todos nosotros debemos volver a decir en este parlamento que ni en españa ni en euskadi hay presos políticos que los presos de eta fueron condenados por delitos perfectamente tipificados

tiene que decir que no pueden calificarse como refugiados vascos a personas huidas de la justicia por haber también cometido una serie de delitos no puede permitir en definitiva permanecer

mientras este personaje se pasea por media europa contando estas mentiras que en fin yo creo que nos humillan o tratan de humillar al conjunto de la sociedad vasca la sociedad vasca no admite estos planteamientos la sociedad vasca no admite estas mentiras

la sociedad vasca es una sociedad digna es una sociedad decente y este

decir claramente estas cosas y ponerse a disposición de esa sociedad vasca digna decente y democrática este es básicamente el objetivo interpelación que usted en fin no diga digamos tampoco demasiadas cosas quizás pero sí esas dos o tres cosas que creo que
usted no solamente debería sino que puede decir perfectamente nada más y gracias eskerrik asko maneiro jauna

el señor arnaldo otegi es el secretario general de un partido político legal

a participar a una sesión a puerta cerrada por un grupo compuesto por nueve parlamentarias y parlamentarios del grupo de los verdes cuatro del grupo de la izquierda europea

se trata de una actividad legal desarrollada dentro de las visitas individuales que contempla el reglamento del propio parlamento europeo es una persona

que tiene derecho a expresar su opinión le han invitado respetando el reglamento ha asistido ha tenido la oportunidad de expresar su opinión e imagino que habrá escuchado también otras no hay nada reprochable desde el punto de vista

al parlamento europeo a raíz de la interpelación que usted plantea hay dos cuestiones que merecen una especial atención en primer lugar la dimensión del acto no ha sido el parlamento europeo el que invitó al señor otegi en su sede el parlamento europeo cuenta con setecientos cincuenta y uno eurodiputados y eurodiputadas en realidad

eurodiputados para asistir a una reunión en una sala a puerta cerrada esta es la dimensión real

no me corresponde por lo tanto pronunciarme sobre las actividades que desarrollan dichos eurodiputados ni sobre el funcionamiento y el reglamento de la eurocámara sí afirmo

por lo tanto la pregunta es la siguiente quién ha actuado en realidad como caja de resonancia de una intervención que era tan limitada en su alcance

la respuesta es que son actores mediáticos y políticos también como usted quienes consiguen amplificar y aumentar la repercusión pública

usted señor maneiro viene a decir que hay que intervenir excepcionalmente ante unas declaraciones públicas

sugiere que deben articularse medidas excepcionales de réplica y creo sinceramente que está equivocado

o con eh bildu son evidentes son habituales son conocidas y estas discrepancias las expresamos aquí en este parlamento vasco y también en el parlamento europeo

lo hacemos con la normalidad del debate diario lo hacemos fijando nuestras posiciones institucionales y defendiendo nuestras propuestas políticas lo hacemos con normalidad con habitualidad en esta misma cámara lo hacemos ante los medios de comunicación y lo hacemos ante la sociedad

y con la que ahora contamos es evidente señor maneiro que mantenemos importantes diferencias con sortu y con eh bildu en relación a la gestión del pasado

o a las decisiones que se deben adoptar para su desarme y disolución definitiva también sobre los pasos que se deben dar y no se terminan de dar en política penitenciaria la posición del gobierno vasco es conocida y reiterada es evidente que no compartimos los principios éticos que no son los mismos es evidente como también lo es que hemos logrado acuerdos y avances también con la izquierda abertzale

de distinto signo y en actuaciones del instituto de la memoria la convivencia y los derechos humanos en otro orden hemos sacado adelante por ejemplo la ley municipal por cierto usted también señor maneiro ahora

no ha tenido ningún inconveniente en unir sus votos a eh bildu siempre que le ha interesado lo ha hecho en muchas ocasiones en esta cámara todo esto es en realidad el reflejo de un país una sociedad y una política que están transitando

y la normalización de la convivencia literalmente señor maneiro me interpela y abro comillas sobre el modo en que pienso hacer frente a las mentiras dichas por arnaldo otegi durante su gira propagandística y que suponen

y le respondo con varias preguntas señor maneiro usted prefiere

o desde la normalidad una respuesta para seguir anclados en el pasado o para avanzar hacia el futuro una respuesta desde las trincheras de la exclusión o una respuesta para una sociedad integrada y con una convivencia inclusiva como lehendakari le garantizo que no aceptaré una construcción basada en el olvido de lo que ha supuesto el terrorismo de eta ni ninguna otra forma de violencia a ese fin orientamos las políticas de clarificación del pasado de memoria y de reconocimiento del daño injusto producido a las víctimas y esta es la premisa básica sobre esa base

se basa en la normalidad democrática la inclusión del pluralismo y el futuro de la convivencia usted conoce mis principios éticos y mi posición política usted conoce también en su intervención inicial no lo ha querido reconocer que ya me he pronunciado sobre las preguntas que usted ha planteado ya me he pronunciado en este foro ya me he pronunciado públicamente incluso hoy hace una semana en una entrevista radiofónica en radio nacional

lo he dicho mire le dejo a usted la distorsión democrática de la excepcionalidad la trinchera de la exclusión y el ancla del pasado evidentemente

en absoluto con la mía ahora bien esto no implica que no reconozca su derecho a exponer sus ideas en el debate político y parlamentario eskerrik asko

sí gracias lehendakari es habitual es tan habitual que es diario que este

o sobre determinadas actuaciones de este gobierno o incluso de otros gobiernos es habitual es diario lo hacemos siempre hay iniciativas de los diferentes grupos

en fin se posicionan en relación a las cosas que han dicho determinadas personas o las cosas que han hecho determinados dirigentes políticos cuando consideramos que estas cuestiones son importantes por lo tanto aquí pedimos lo mismo porque estamos hablando de un tema que nos afecta directamente es el tema

de la democracia del respeto a las víctimas del terrorismo de hacer justicia de no permitir que nadie pretenda

excepcional no pedimos ninguna respuesta planteada desde las trincheras no no lo que pretendemos es que usted y este parlamento se posicione en relación a una serie de declaraciones que nosotros consideramos indecentes e impresentables realizadas por el señor

eso es lo que planteamos pero con absoluta normalidad y lo normal es pedirle a usted que en este parlamento además de contarnos todo lo que nos ha contado sobre quién es otegi cómo fue al parlamento europeo

en lo importante en lo que yo le he preguntado es decir que se posiciones en relación a las declaraciones realizadas por cuando afirma que hay presos políticos usted está de acuerdo con esta

considera que hay refugiados vascos en el extranjero esto es sobre lo que yo le pregunto y creo que usted y su gobierno y el parlamento vasco por inmensa mayoría debería decir que no hay presos políticos y que no hay refugiados vascos básicamente esto y alguna cosa más pero desde la más absoluta normalidad democrática ya sabemos que hay discrepancias políticas o que ustedes tienen discrepancias políticas con otras formaciones políticas

no me diga que yo coincido en el voto en algunas ocasiones con los representantes de

sentido esto en fin está fuera del debate que yo le he planteado estamos hablando de cosas mucho más serias estamos hablando

de un delincuente de un colaborador de eta

se ha paseado por europa tratando de blanquear la historia criminal de eta eta es una banda terrorista que atacó principalmente a ciudadanos vascos usted

a la palestra pública a decir que esas declaraciones son impresentables y son indecentes pero es lo que haría cualquier demócrata no haga cálculos

de todos los vascos por lo tanto tiene que comportarse en primer lugar

lo que tiene que decir es que son inaceptables y que no va a permitir que intente blanquear la historia de eta y que no hay presos políticos

refugiados vascos esto es lo que tiene que decir dos o tres cosas usted acusa nos acusa o acusa a determinadas personas de hacer de caja de resonancia la señora jiménez becerril ha hecho de altavoz de otegi está diciendo eso porque le dijo a la cara que

lo mató eta en españa no había ninguna guerra había democracia

igual que resulta imposible imaginar a este parlamento acogiendo y dando la palabra a un terrorista yihadista que hubiese sido condenado por los atentados del metro y el aeropuerto de bruselas

de la democracia europea pero es que esto lo tiene que decir todo demócrata y usted lo tiene que decir porque está haciendo referencia

que atacó principalmente a los ciudadanos vascos y usted como representantes de los ciudadanos vascos

lo que tiene que hacer es actuar con mayor naturalidad no piense en las elecciones diga claramente que estas

para que este parlamento diga eso que creo que una sociedad democrática debe decir eskerrik asko maneiro jauna lehendakari jauna zurea da hitza

señor maneiro si yo digo lo que pienso es que pienso en elecciones y si usted

es habitual es diario es ordinario ha dicho usted

es diario es ordinario que yo como lehendakari me posicione ante los hechos

ante toda la audiencia del estado español que pudiera seguir la entrevista en radio nacional no tengo por lo tanto nada más que decir salvo que escuchada su intervención

aquí me he posicionado aquí tanto que usted gesticula en este momento para que yo diga aquí lo que ya he dicho en reiteradas ocasiones

en plenos monográficos en actuaciones también en relación a las víctimas del terrorismo

escuchada su intervención voy a hablar muy claro creo sinceramente que hay una gran dosis de demagogia en sus intervenciones para usted la preocupación central no son las víctimas su interés se centra en realidad en exprimir las posibilidades de lograr presencia mediática

es lo que viene haciendo pleno a pleno desde hace cuatro años sin querer hacer caso a lo que en este pleno el lehendakari y los parlamentarios y parlamentarias del grupo nacionalistas vascos constantemente estamos diciendo en base a nuestros principios éticos en base a nuestros principios políticos en base a lo que es la verdadera historia usted se muestra escandalizado

un cambio con respecto a lo que ya existía en el propio parlamento europeo sí señor maneiro también sobre esto en la justificación de su interpelación le recuerdo que la izquierda abertzale tiene su propio europarlamentario

opiniones similares a las que ofreció el señor otegi solo que en lugar de hacerlo

el europarlamentario lo hace en el hemiciclo ante setecientos cincuenta y uno eurodiputadas y eurodiputados señor maneiro

usted ha dicho aquí en esta misma tribuna en su intervención última hoy

usted lo ha dicho y habrá quedado grabado hablemos en presente y hablemos de cara al futuro

que trataron de impedir su presencia y su palabra y la respuesta fue contundente y la dio el propio presidente del parlamento europeo

quien respondió lo siguiente a quienes planteaban la prohibición comprendo sus sentimientos pero contra este tipo de invitaciones individuales no puedo actuar

usted señor maneiro hoy vuelve a sobreactuar pero a lo largo de estos últimos años

y le molesta que yo se lo recuerde en la primera intervención no ha tenido inconveniente alguno en unir sus votos a ese grupo político al que hoy se refiere como el encargado

de eta lo ha vuelto a decir usted aquí en su intervención usted ha unido en múltiples ocasiones los votos de upyd con los votos de eh bildu y lo ha hecho usted aunque quiera ocultarlo con estratagemas de procedimiento técnico parlamentario señor maneiro todas y todos los parlamentarios lo sabemos perfectamente en esta cámara señor maneiro

consiste en que la respuesta de la sociedad y la política se base en la normalidad democrática la inclusión y el futuro de la convivencia todo ello

una memoria que recuerde y afirme que matar estuvo mal

fue injusto esto es lo que exijo y esta es la hoja de ruta firme clara y sostenida desde el primer día por parte de este gobierno

el encuentro social es el valor mayor al que orientamos nuestra actuación se lo debemos a las víctimas se lo debemos a las nuevas generaciones y se lo debemos también a la generación de nuestros mayores necesitamos una paz

necesitamos una convivencia con memoria y este es el encuentro social este es el proyecto estratégico de país y de sociedad que defiende este gobierno

señor maneiro pero esta va a ser la respuesta que reciba de este gobierno

normalización y encuentro social eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

bota zenien pensar en salir al exterior

o es que no le parece que la situación para la juventud vasca es muy complicada

el sesenta por ciento de la juventud no tiene ingresos

en la pobreza son menores de treinta y cinco años pero además las personas jóvenes que acceden a un empleo no tienen una situación mucho más favorable el veintidós por ciento de las personas jóvenes con trabajo no llega a fin de mes

son temporales y el cuarenta y dos por ciento son de menos de un año las personas jóvenes tienen más probabilidad que el resto de ser despedidas la proporción es de uno a seis

y el resto de las personas trabajadoras y mucho más aún

y mujeres y ante todo esto su gobierno no es que no haya priorizado contemplado una política eficaz dirigida a la juventud sino que además

tiene usted algo de empatía en serio quiere plantear como una oportunidad el tener que salir fuera

que estamos en precampaña nos prometa hoy mismo pues un listado

cuatro años muchas de ellas las mismas que prometieron entonces a la juventud en su día en las últimas elecciones

también autocrítica aurreko guztiarengatik

hoy dos de cada tres empresas afirman que necesitan nuevas contrataciones y un cuarenta y cinco por ciento de las necesidades están relacionadas con la formación profesional especializada

dice usted que no tenemos medidas en esa reunión a la que usted se refiere expliqué que la política económica de gobierno consiste en centrar las iniciativas

las nuevas tecnologías los servicios de atención a las personas y su calidad el sector de comercio turismo y ocio activo

nuestra responsabilidad es también centrar la orientación de la formación en este sentido bigarren neurri bat aipatuko dizut gazteei zuzenduta hau da

todas las instituciones públicas trabajamos juntas en el plan de emprendimiento para ofrecer formación y asesoramiento respaldo financiero y avales ayudas para la internacionalización en la reunión a la que usted se refiere expliqué que hemos tomado medidas a través del programa

o del apoyo a la junior cooperativas y desde luego las personas jóvenes emprendedoras cuentan con todo el apoyo público cuando adopten la decisión de poner en marcha una actividad

somos muy conscientes de la necesidad de empleo que tiene la juventud sin empleo no hay futuro ni para ellos ni ellas ni para el país

hay mucho trabajo por delante pero también hay que reconocer que estamos avanzando se crea empleo en euskadi por primera vez la juventud forma parte de esa recuperación de empleo

somos conscientes así lo expresé en la citada reunión que es importante que el empleo sea de calidad y ese es el objetivo más duración mejores condiciones parte de este objetivo lo vamos a conseguir si la industria sigue siendo el motor del crecimiento en euskadi

dos puntos por encima de la media lo es también porque ha comenzado a generar empleo el mes pasado

en la reunión a la que usted se refiere señora zulaika pude destacar que nuestro que la juventud tenga oportunidades en las empresas vascas esa es la prioridad esto no significa renunciar ni denostar a quien quiere tener una experiencia de trabajo internacional abordemos bien los conceptos el drama es que alguien se vea obligado a salir por no tener oportunidades aquí sí

la oportunidad de tener una experiencia internacional una experiencia en las empresas vascas en el exterior o en empresas que le aporten valor experiencia que le sirva para ampliar sus capacidades profesionales que les permita desenvolverse en el ámbito internacional este es un valor para un país y para unas empresas vascas cada vez más abiertas al mundo pero insisto el objetivo es que la juventud tenga oportunidades en las empresas

estén aquí o estén internacionalizadas como país el objetivo es que esa experiencia la puedan retornar a la economía vasca

para eso es necesario crecer crear empleo y que sea de calidad el objetivo del gobierno vasco y de todas las instituciones es impulsar la reactivación económica en euskadi y el empleo en euskadi pero tenemos que saber que la economía vasca está internacionalizada y que a más apertura más crecimiento aquí por eso impulsamos el objetivo de que mil setecientos cincuenta pequeñas y medianas empresas se internacionalicen

por eso el programa global lehian de apoyo a la internacionalización de la empresa vasca por eso ofrecemos cuatrocientos cincuenta becas

en el extranjero nos interesa que las empresas vascas se internacionalicen

nos interesa que cuenten con la juventud vasca para trabajar para contribuir a desarrollar estos proyectos y en todas mis intervenciones públicas señora zulaika ante el mundo de la empresa

incorpore a la juventud porque significa incorporar conocimiento creatividad capacidad tecnológica y también una visión más abierta del mercado global la juventud vasca es nuestra mejor materia prima es nuestra garantía de futuro

el mundo de la empresa tiene que ser capaz de aprovechar este talento y esto es todo lo que dije en esa conferencia o en esa reunión a la que usted ha apelado

eso es lo que he dicho que dijo o sea que ven como una oportunidad salir fuera

hace no mucho el señor consejero decía todo lo contrario decía el señor consejero el señor toña decía

reconocía que la situación de aquí evidentemente las cosas no están muy bien los jóvenes han empezado a salir de aquí y nosotros no queremos

eso es lo que decía el señor consejero y por el contrario justo esta semana el señor lehendakari insta o anima a los jóvenes a buscar también una oportunidad fuera por favor pónganse de acuerdo yo por lo menos igual me quedo si bien considero que no fueron afortunadas aquellas palabras

así lo entendió prefiero quedarme con las palabras de toña porque por lo menos reconocía que la situación no era buena y que había mucho por hacer no voy a hablar hoy delas últimas palabras creo que esta mañana ya se ha hablado bastante del señor viceconsejero respecto a lanbide

en la búsqueda de intermediación laboral de todas las personas de las personas jóvenes también

creo que con esos mensajes por supuesto que el mercado empresarial no solamente el empresarial el mercado hoy en día es un mercado global a nivel internacional pero esos mensajes entendemos que tampoco ayudan a las empresas se aquí

experiencias laborales no siempre invitan a las empresas de aquí a contratar directamente a las personas jóvenes que tras su formación han recibido la formación práctica y las prácticas necesarias

como estamos en un mercado global podemos animar a los jóvenes a ir a estudiar a finlandia porque menudo nivelazo que van a adquirir

o podemos animar a los jóvenes que se vayan a china para aprender chino porque también las empresas de aquí están en china pero trabajando con las condiciones de allí

el contexto y entendemos perfectamente sus palabras lo que no entendemos

que tiene la juventud vasca señor lehendakari

esas lindezas ha comentado algunos de los programas que ha puesto en marcha desde el gobierno sí los conocemos nosotros también

y también hemos opinado al respecto también hemos compartido al respecto con la juventud y con los

lo que piensan se reconoció los errores del primer lehen aukera los primeros errores que salieron al ponerse en marcha y se rectificó en gran parte de ellos eso también lo reconocimos y se lo reconocemos hemos preguntado y nos hemos interesado por el programa hazilan porque creemos que es

que habría que poner en marcha y ese es el ikuspuntu que para eh bildu creemos que hay que tener en cuenta trabajar desde lo global desde el ámbito comarcal potenciando también a los jóvenes en el ámbito local y en ese sentido creemos que podría ser un gran programa pero así y todo con todos esos programas todavía ante esta situación ayer lo decíamos también

las medidas tienen que ser mucho más eficaces para eso el

y hay que ser valientes y hay que afrontar la situación que tiene la juventud están bien algunos de esos programas pero demuestran que

y hoy quiero se me acaba el tiempo pero quiero aprovechar para pedirle al señor lehendakari que ya que les pide a aquellos jóvenes que consideren la oportunidad de marchase fuera luego con el reto evidentemente

a este país le pido que pongan también todas las medidas para que todos los que quieran volver los talentosos y los que no tienen tanto talento puedan hacerlo y puedan volver

unas condiciones de vida dignas y puedan tener un empleo digno aquí también eskerrik asko zulaika andrea lehendakari jauna zurea da hitza

eskerrik asko legebiltzar buru andrea señora zulaika no sé si

no sé si conseguirá entender usted lo que por dos veces he dicho en mi primera intervención y es que nuestro objetivo es que la juventud tenga oportunidades en las empresas vascas

estén aquí las empresas vascas o sean empresas vascas internacionalizadas

veo que reconoce lo que pueda ser el programa lehen aukera no obstante

lo que es el programa lehen aukera o hazilan al que usted ha hecho referencia como también

veo que creo que tiene una confusión todavía no obstante en el programa lehen aukera al hablar de subvenciones mire nuestro compromiso con el empleo juvenil es

y ha apelado usted a los presupuestos y como muestra le diré que en los presupuestos de este año dos mil dieciséis

acciones e iniciativas dirigidas a mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes y este importe se destina a programas de apoyo al emprendimiento juvenil programas de formación dual en la formación profesional el programa hezibi

programas de acceso al mercado laboral como lehen aukera programas de fomento del contrato de relevo berriz enpresa para favorecer la incorporación de las nuevas generaciones a la actividad comercial

en acuerdos con las universidades vascas la formación profesional y con fundaciones privadas para incentivar la inserción laboral de las personas jóvenes y fruto de estas iniciativas esperamos facilitar la empleabilidad de veinte mil personas jóvenes este año

de nuestro compromiso por que las personas jóvenes encuentren trabajo en euskadi eusko jaurlaritzak bere eginkizunarekin jarraituko du

señoras y señores consejeros señorías buenos días

buscar información además siempre la actuación y la presencia de asesores en los gobiernos ha sido una cuestión

utilizada de una manera u otra muchas veces

que realizan o no o por su dedicación a otras cosas diversas a veces por su cantidad en los gobiernos

los ciudadanos y las ciudadanas de este país han leído en relación con cuestiones que después de alguna obligación de publicación

asesores y de sueldos y nosotros desde luego no vamos a entrar en nombres

asesores de que un número de asesores del gobierno vasco cobran sueldo

viceconsejero y eso claro eso supone

supone que algunos asesores del gobierno vasco cobran un sueldo superior al del presidente del gobierno de españa entonces

que sea una cuestión de reflexión o de información cuáles son los criterios defendidos por el gobierno que usted preside para entender como procedentes

a personal asesor nombrado con rango de viceconsejero vuelvo a decir es una cuestión que está en la prensa que los ciudadanos y las ciudadanas de este país lo han leído que en una época como esta donde estas cuestiones son

ante preguntas formuladas aquí por parte de los grupos parlamentarios en todo caso voy a empezar por una precisión porque afirma usted en su justificación de la pregunta que la exigencia de la transparencia

no lo ha dicho en su intervención pero está escrito en su justificación de la pregunta y quiero matizar que la ley de transparencia del estado es de diciembre

y funciones de sus altos cargos pero esta obligación en la ley de transparencia del estado

en euskadi la información relativa a los altos cargos personal eventual o asesores está publicada en el portal de acceso a los datos del gobierno vasco open data

dos mil once y cuenta con datos desde el dos mil nueve hasta hoy

su plena accesibilidad por lo que hace referencia al gobierno español las retribuciones de los asesores han sido por lo tanto secreto de estado si puede decirse de esta manera hasta el día doce de enero del dos mil quince en euskadi desde el año dos mil nueve se viene publicando mire en cuanto a los criterios de retribución aplicados por el gobierno vasco por los que usted pregunta le puedo decir que son

estables y transparentes coherentes porque hay una relación progresiva entre responsabilidad y funciones con la retribución estables

los mismos que vienen siendo en esa progresividad con los que eran en la legislatura anterior con el gobierno anterior que usted apoyaba con una única diferencia señor barrio que ahora el número de altos cargos y asesores es un veinte por ciento menor con respecto a lo que era en la legislatura

y transparentes porque son públicos y están publicados con claridad desde hace cuatro años eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna barrio jauna zurea da hitza

gracias señora presidenta gracias lehendakari yo

controlará al gobierno de españa en relación con las necesidades de transparencia pero yo tengo que controlar a este gobierno y quiero decir que

que asesores de su gobierno cobren más que el presidente del gobierno de españa eso le parece bien estamos en una época que hay que hacer gestos

gestos a veces tenemos que hacer reflexiones críticas con que no sabemos responder a la ciudadanía con gestos por nuestra parte

en relación con las cuestiones de pulcritud en relación con cuestiones de proporcionalidad a usted le sigue pareciendo bien que

y vuelvo a decir no quiero dar nombres y tenga responsabilidades de gobierno o no que trabaje en ámbitos políticos y que cobre más

en ese sentido si es proporcional si es pulcro de cara a la ciudadanía

que cobren un sueldo mayor que el presidente del gobierno de españa dígame por favor

eskerrik asko legebiltzar buru andrea hombre señor barrio no me venga usted con que

el control al gobierno español se sustancie cuando usted me está preguntando por los criterios de retribución en comparación con lo que es el sueldo del presidente del gobierno español mire

que en el gobierno español un gran número de asesores y altos cargos cobran más que el presidente del gobierno español y no le voy a decir lo que pienso del sueldo del presidente español pero el director de su oficina económica

el secretario de presidencia el director de asuntos internacionales la directora secretaria técnica de la comisión delegada el director del departamento de seguridad del gobierno español entre otros muchos cobran mucho más que el presidente español y este es un ejemplo de coherencia

del gobierno español si es coherente la retribución de sus altos cargos en relación a lo qué es la retribución

no me parece un modelo de referencia y por lo tanto defiendo los criterios de la administración pública vasca que son coherentes estables y transparentes

estables porque le recuerdo que son los mismos del gobierno anterior que usted apoyaba señor barrio y transparentes porque son públicos y están publicados con claridad desde hace cuatro años

egun on guztioi madrugada trece de enero de dos mil diez un terremoto sacude haití esa misma tarde el gobierno vasco presidido por el lehendakari patxi lópez ya ha habilitado una partida de doscientos mil euros

y pone a disposición de la agencia española de cooperación grupos electrógenos equipamientos y equipos de rescate médicos una unidad logística y dos grupos de especialistas

más ayudas siete de noviembre de dos mil trece huracán en filipinas

el gobierno vasco el que usted preside señor urkullu cuatro jornadas después

ya en dos mil catorce y de esto tuvimos ocasión de hablar usted y yo en esta misma cámara a finales de noviembre de dos mil trece dieciseis de abril de dos mil dieciséis

este parlamento como otras instituciones guardó un minuto de silencio solidario con las víctimas a día de hoy no hay rastro de que se haya activado ninguna ayuda de emergencia ni que se hayan movilizado recursos no sabemos si se ha hecho algo al menos no tenemos noticias de ello

y que no se haya llamado a la movilización de recursos de que no se haya

con los que cuenta en los presupuestos suele ser indicativo de que no se ha hecho nada el portavoz de su gobierno señor lehendakari

pero no de esas ayudas como también debería ser sí sabemos porque eso se publicó que el día veintiséis de abril el gobierno aprobó la convocatoria de ayudas a acciones humanitarias

por un importe de tres coma dos millónes de euros los socialistas creemos que el sentido mismo de las ayudas de emergencia es el de poder ser activadas

a lo largo del año si se activarán desde enero estarían disponibles en cualquier momento

por ello le pregunto por qué el gobierno vasco no ha puesto en marcha de forma inmediata la concesión de ayudas de emergencia
para la zona de ecuador afectada por los terremotos a pesar de contar con presupuesto habilitado para ese fin eskerrik asko unzalu jauna erantzuteko lehendakari jauna

el hábito de recurrir a la comparativa con el gobierno anterior cosa que respeto lo que sí me parece es que está usted confundiendo algunas de las cuestiones el gobierno vasco sí ha puesto en marcha la concesión de ayudas de emergencia y lo ha reconocido usted lo que pasa es que lo hacemos con un procedimiento pautado y transparente que responde a una política coherente y sostenida que es de lo que se trata

también de las de emergencia usted ha dicho y esta semana se ha publicado en el boletín del país vasco la convocatoria de ayudas de emergencia y tenemos una sensibilidad clara para ecuador pero también para otras necesidades de ayuda y por favor señor unzalu

el lehendakari se pone en primera instancia en comunicación con la representación diplomática del país donde haya sucedido esa emergencia para saber

mire contamos con una línea de financiación permanente para ayudas de emergencia y acción humanitaria

y también con una línea de financiación de estrategias marco de acción humanitaria de dos millónes de euros y estas ayudas son una

lo que sí me interesa decir en relación a estas cuestiones es

pasan a un segundo plano en un periodo de tiempo relativamente escaso relativamente escaso y sin embargo sus consecuencias se prolongan en el tiempo y es ahí

donde nuestra cooperación debe estar siempre con el principio de complementariedad y es como trabajamos en este gobierno eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna

reproduciendo el debate de noviembre de dos mil trece porque yo le vuelvo a decir lo que le dije en aquella ocasión señor lehendakari no estaba activado el decreto efectivamente se ha activado el día bueno lo aprobaron ustedes el día veintiséis de abril y se ha publicado el cuatro de mayo y a partir de ahora efectivamente hay líneas de actuación de un millón doscientos mil y dos millónes en las dos formas de ayuda de emergencia lo que yo

en noviembre de dos mil trece es que este tipo de mecanismos tienen de estar activados desde enero como se hizo en enero de dos mil diez

ya sé que usted se habrá puesto bueno ya sé usted me lo ha dicho y yo se lo creo por supuesto que se ha puesto

en contacto con la delegación diplomática de ecuador en euskadi

actuar inmediatamente con los medios adecuados para tratar de paliar los efectos de la catástrofe

como se ha hecho en otras ocasiones para conocer las necesidades en el lugar del desastre tampoco se ha puesto usted en contacto con las asociaciones

y lo que le estoy diciendo es que usted utilice las herramientas que el propio estatuto y el que autogobierno le da para que puedan actuar y que euskadi a la cabeza y sea un referente en cuanto a cooperación de ayuda humanitaria y cooperación al desarrollo que sinceramente su gobierno está dejando muy atrás lo que se había ganado

legebiltzarburu andrea señor unzalu yo le agradecería un poquito más de rigor en las apelaciones personales que hace usted cuando dice que no me he reunido o he dejado de reunirme señor unazlu estamos recibiendo las solicitudes y en breve plazos se harán efectivas las ayudas para paliar las crisis humanitarias

cuándo dice usted que aprobamos el decreto en el consejo de gobierno veintiseis de abril cuándo fue la catástrofe en ecuador

preguntar primero a la delegación diplomática cómo podemos ayudar desde el primer momento no de manera repentina según las ocurrencias

contamos con las dotaciones económicas y las estamos poniendo a disposición a través de los cauces habituales de gestión de las convocatorias de ayudas quiero recordarle que la estrategia y las líneas de actuación de la agencia vasca de cooperación se contrastan y comparten con las ong que se encuentran trabajando sobre el terreno que estas organizaciones demandan una estrategia de largo y medio plazo son las

las que demandan esa estrategia de medio y largo plazo

de las personas afectadas por la crisis y reforzar sus capacidades para superar las dificultades pero con un esfuerzo prolongado en el tiempo no de tal manera que vayamos en una estrategia de acción repentina

sí gracias presidenta señora consejera

han vivido otra jornada de altercados durante una protesta

en leioa un grupo de violentos asaltó el rectorado y provocó lesiones a un vigilante y destrozos varios en vitoria los participantes en la protesta

con estas actuaciones el sindicato estudiantil reclamaba que se anulen los expedientes disciplinarios abiertos y las imputaciones a varios alumnos por los graves disturbios ocurridos el pasado diecisiete de marzo en vitoria y bilbao durante la celebración de una huelga

en una batalla campal la upv ha condenado estas prácticas violentas y tanto el lehendakari como el parlamento vasco representantes de la ciudadanía vasca deben igualmente condenarlas dado que no es admisible que estas prácticas se reproduzcan a lo largo del tiempo estos actos violentos son

contundentemente censurados por las instituciones democráticas una cosa es obviamente

determinadas ideas o protestar ante determinadas decisiones de los diferentes gobiernos y otra muy diferente totalmente inaceptable es llevar a cabo actos violentos para presionar a las instituciones porque además estos hechos son continuación de hechos anteriores igualmente violentos por ello

violentos que se repiten en euskadi cada cierto tiempo y que son absolutamente inaceptables esta interpelación tristemente se ha visto reforzada por otro ataque provocado tras su presentación en lo ocurrido en la madrugada del dos de mayo cuando desconocidos intentaron quemar

de álava la realidad es que los violentos han desplegado en los dos últimos meses toda una estrategia contra la universidad pública vasca

localiza material para sabotajes bengalas y botellas con gasolina en las proximidades del campus vitoriano pocos días después

pararon un autobús lo pintaron volcaron contenedores y colocaron pancartas el diecisiete de marzo en una supuesta jornada de lucha contra la lomce grupos de radicales

graves destrozos en varias facultades alavesas y después se dirigieron hacia el centro de vitoria donde protagonizaron una batalla campal y daños materiales que se acercaron

reaccionó denunciando estos hechos y abrió varios expedientes a estudiantes involucrados en estos incidentes la organización ikasle abertzaleak

bajo el lema erasorik ez contra los expedientes abiertos a varios estudiantes de ingenieros de san mames y del campus de álava el resultado el mismo

y en el campus de leioa donde además agreden a los vigilantes jurados y provocan diversas contusiones y heridas a siete de ellos

de la puerta del vicerrectorado del campus de álava el denominador común de todos estos ataques e incidentes es la organización ikasle abertzaleak este supuesto sindicato estudiantil aparece siempre en las jornadas de protesta en las algaradas y en los ataques violentos lo dejan claro sus propios lemas y eslóganes como queda demostrado con el lanzado para la jornada

y construir destruyendo muy significativo y muy clarificador de lo que busca esta organización estos han sido los hechos un relato que nos retrotrae a fechas pasadas cuando la violencia era una constante no solo en la universidad y una herramienta perfectamente diseñada por

amedrentar a todos aquellos que no pensábamos como ellos un mecanismo de refuerzo de la estrategia de limpieza ideológica llevada a cabo durante medio siglo por la banda terrorista eta no es admisible que las prácticas violentas se reproduzcan

cualquier acto de violencia es inadmisible e injustificable en democracia todos los demócratas de forma individual y colectivamente en las instituciones debemos tener como bandera la contundente condena de los actos violentos apoyar el aislamiento social de quienes protagonizan estos hechos y propiciar su persecución por las fuerzas policiales

las fuerzas democráticas de este parlamento consensuamos una declaración de condena en la que señalábamos que asaltar centros universitarios

destrozar bienes públicos y sembrar el caos en las calles son actuaciones incompatibles con el derecho democrático a la manifestación y la protesta este pronunciamiento no se pudo convertir en declaración institucional del parlamento porque quienes desde hace décadas han venido apoyando y dando cobertura

a la propia universidad que a nuestro juicio no ha sido lo suficientemente contundente con estos individuos que periódicamente siembran el caos y

académico esto no solo lo pensamos nosotros algún sindicato lo ha hecho público estos días y son muchos los docentes que lo han denunciado y que lo siguen denunciando se dice que hay un acuerdo entre la upv y el departamento de seguridad para que la ertzaintza no actúe en los campus universitarios a no ser que lo requiera el rectorado y para que en estos incidentes de los últimos meses a pesar de su gravedad

por eso interpelamos al gobierno inicialmente al lehendakari aunque sabemos que va a responder la consejera de seguridad para saber qué piensa hacer para acabar con estos incidentes violentos que se repiten en la universidad vasca cómo piensa actuar contra quienes los protagonizan y contra quienes los amparan actuaciones van a llevar a cabo para impedir que estos incidentes vuelvan a repetirse no basta con lamentarlos después no basta siquiera con condenarlos al gobierno hay que pedirle que antes de que se produzcan los
y por lo tanto esa es la interpelación que nosotros realizamos gracias eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko beltrán de heredia andrea zurea da hitza

legebiltzarkideok efectivamente señor maneiro la utilización de algún tipo o modo de violencia sea del grado que sea en el supuesto

es intolerable y es inadmisible lo es hoy lo era en el pasado y lo será siempre el uso de la violencia cuanto más grave sea más desvirtúa

o cualquier otro argumento legítimo que se pretenda defender las reivindicaciones manchadas de violencia son inadmisibles en una democracia y estos actos violentos efectivamente deben ser censurados y rechazados por todas las instituciones democráticas

representamos políticamente a la sociedad y también por la propia sociedad en su conjunto estamos de acuerdo señor maneiro

creo sinceramente que ante los últimos acontecimientos todas las instituciones públicas afectadas se han expresado en este sentido de una manera contundente y unánime y evidentemente así lo ha hecho la propia universidad así lo ha hecho este gobierno en especial el departamento de educación

es bueno es didáctico es ejemplar es eficaz que en esto también demos una imagen de unidad porque discrepar protestar rechazar determinadas medidas o decisiones reivindicar medidas alternativas exigir rectificaciones nada de eso es compatible ámbito académico universitario ni en cualquier otro ámbito con querer hacerlo ejerciendo la violencia sobre las personas o sobre los bienes sean estos públicos o sean privados que se haga en el ámbito educativo en el ámbito universitario nos da qué pensar porque naturalmente asociamos

de expresión y nos da qué pensar porque naturalmente asociamos la educación de nuestros y nuestras jóvenes con el deseo de no cometer los errores del pasado y con el deseo de que en un futuro de convivencia

segura de convivencia en bienestar en definitiva

ellos y ellas para nuestros jóvenes es verdad que desde febrero de este año estamos siendo testigos de una dinámica de protestas en el ámbito

desde el punto de vista del conocimiento policial desde las primeras protestas de marzo de carácter meramente estudiantil hasta las más recientes las que se

en este mismo mes y que han coincidido con protestas y acciones estudiantiles con otras que están más relacionadas con el mundo laboral y en concreto con el día del trabajo en total señor maneiro se han registrado

veintiséis acciones la mayoría de ellas son pintadas sabotajes pinturas

también ha habido ocupaciones de aulas encadenamientos y diversos destrozos materiales

a todas estas acciones hay que añadir otras que han tenido un componente más violento generando

y en el de gasteiz y en el entorno también de algunas manifestaciones y efectivamente uno de los más recientes fue el de la utilización de líquido inflamable

puerta del vicerrectorado de la upv de gasteiz y también ha habido otros dos casos que usted mismo ha enumerado más graves de agresiones a personas agresión a agentes de seguridad

que fueron a controlar la situación y esta información señor maneiro

ha activado para proteger las manifestaciones y evitar como ha evitado que los incidentes de orden público

alcanzaran una mayor gravedad y forma parte también de las diligencias de investigación que están abiertas para esclarecer estos hechos delictivos

en las que no ha habido identificaciones todavía o imputaciones y esta es la labor policial esto es lo que nos corresponde hacer hoy como nos ha correspondido hacerlo siempre y que contribuye a que cada vez seamos también más eficaces en la prevención prevención desde la información protección desde la información y persecución

insisto nada absolutamente nada justifica que se recurra al uso de la violencia para expresar el malestar ante determinadas medidas o el rechazo ante determinadas decisiones y menos aún en este ámbito en el que las personas se están preparando y desarrollando

y el debate científico un debate constructivo que haga avanzar esta sociedad en parámetros de bien común y en esto coincidimos todo el gobierno y coincidimos

y que reflexione sobre su incidencia y evolución y coinciden también todas las instituciones afectadas con la totalidad del mundo académico y educativo al frente para el departamento de seguridad y para la

es el trabajo policial preventivo de protección investigación y persecución que desarrollamos día a día es lo que tenemos que hacer siempre

para cortar y para perseguir cualquier riesgo de violencia que se detecte y evidentemente para detener aquellas personas que alienten que cometan o bien que den cobertura a este tipo de actos y esta es fundamentalmente la labor de la ertzaintza prevenir y perseguir el delito

también insisto más allá de las funciones policiales de seguridad que tenemos encomendadas sigue siendo fundamental la colaboración ciudadana y en este caso la colaboración del colectivo estudiantil para atajar este tipo de provocaciones

ni son datos significativos numéricamente en el conjunto de los ilícitos penales que se registran habitualmente de hecho en la estadística de ilícitos penales conocidos por la ertzaintza la tasa delictiva

y los actos de violencia asociados a las protestas

no han desvirtuado esa tendencia al contrario ya nada tiene que ver con lo que ocurría tan solo hace seis siete u ocho años en los que teníamos tasas de doscientos cincuenta incidentes de orden público y actos de violencia callejera por año y muy lejos por supuesto

pero tenemos que insistir en ello es fundamental la sensibilización generalizada de que la violencia genera violencia y de que la violencia desvirtúa cualquier intento de entendimiento sea cual sea la causa del desencuentro

hoy ese trabajo de sensibilización es el mejor dique de contención para contener estos actos de agitación por eso junto a la labor policial de prevención de persecución de investigación que es lo que le toca hacer a la ertzaintza que es lo que está haciendo

y en este caso en colaboración directa e inmediata con las universidades efectivamente atendiendo a ese protocolo de colaboración y a ese protocolo de intercambio de información

esta tendencia a la violencia es el firme rechazo social el firme y unánime

consejera ha realizado usted un buen discurso que nosotros compartimos habitualmente cuando yo

se pone a la defensiva y se indigna pero no se indigna con los violentos no se indigna con

con los que provocan altercados sino que se indigna con un servidor por el hecho de preguntarle sobre estos asuntos

en este caso pues no ha sido así y efectivamente me alegra usted ha sido contundente dialécticamente con estos hechos ocurridos y ha apuntado algunas buenas ideas sobre lo que debemos hacer para que no vuelvan a producirse sin embargo quiero decirle que

se han producido ya y entonces yo le pregunto exactamente qué es lo que va a hacer el departamento si pudiera concretar más algún tipo de actuación para que estos hechos no vuelvan a ocurrir es decir si se han producido estos hechos altercados violentos ataques

supongo yo entiendo yo que alguna responsabilidad también tendrá el departamento de seguridad algo habrá fallado usted apuntaba efectivamente a la prevención a la información a la persecución y a la investigación que son tareas que deben llevar a cabo

el rechazo social y la concienciación ciudadana pero seguramente haya algo que mejorar

porque estos hechos se han producido y puede que vuelvan a ocurrir en el futuro por lo tanto algo habrá que mejorar en las actuaciones llevadas a cabo

la prevención la información la investigación y la persecución

mucha información en la universidad se conoce todo el mundo

de estos altercado y por lo tanto yo le exijo que movilice su departamento que movilice para que estos hechos no puedan volver a ocurrir no basta con condenarlos ni siquiera basta con detener después

hay que adelantarse a los acontecimientos y hacer todo lo posible para que estos hechos no puedan volver a ocurrir no podemos permitir que los radicales

y campen a sus anchas por los campus universitarios vascos señora consejera no podemos permitir que los radicales conviertan la universidad en su feudo

hasta ahora que los responsables de la propia universidad incluso hayan mostrado la contundencia suficiente para afrontar el problema creo que se puede hacer algo más por parte de la universidad y también por parte de su departamento además de la condena que todos los demócratas hemos expresado sincera y contundente le exigimos al gobierno que actúe decididamente que se involucre con todos sus medios para aislar a los que provocan estos actos violentos para detenerlos y llevarlos ante la justicia para devolver a la universidad que merece para desarrollar dignamente su actividad docente e investigadora

intervención se dice que hay un acuerdo entre la upv y el departamento de seguridad

actúe en los campus universitarios a no ser que lo requiera

y parece que en estos incidentes de los últimos meses a pesar de su gravedad no ha sido requerida la actuación de la policía vasca queríamos saber si efectivamente esto es así si hay algún tipo de acuerdo para que la ertzaintza no actúe en los campus universitarios hay que

los complejos hay que actuar evidentemente de manera democrática pero también de manera contundente hay que adelantarse a los acontecimientos además de condenarlos

le quería hacer seguramente compartimos lo básico y lo fundamental nuestra condena

democrático a esta serie de actuaciones pero claro usted como responsable del departamento de seguridad seguramente podrá hacer algo más para que estos hechos no vuelvan a producirse en todo caso presentaremos la correspondiente para que este parlamento condene estos hechos e inste al departamento de seguridad a que tome todas las medidas necesarias para que no puedan volver a producirse

la universidad pues mire hoy más que nunca la comunidad educativa tiene en todos los niveles un grado de sensibilización concienciación y participación activa en la reconstrucción

la elaboración del plan de paz y convivencia liderado por la secretaría de paz y convivencia contó desde el comienzo con la colaboración

y una de las iniciativas recogidas en el plan abordar específicamente la contribución compartida de las universidades vascas

fruto de esa estrecha colaboración entre el gobierno y la comunidad educativa son ya muchas las iniciativas que han llegado desde la propia universidad y que han llegado también a los centros

adi adian hasta la fecha se han desarrollado ciento treinta y tres sesiones con más de cinco mil alumnos y alumnas participantes en el ámbito universitario

impulsó también el proyecto ahotsak para promover entre el alumnado la reflexión sobre el terrorismo la violencia las vulneraciones de derechos humanos

durante este año también se desarrolló una experiencia piloto en la que participaron doscientos ochenta alumnos y alumnas de las tres universidades experiencia que

expresa de los centros educativos se están impartiendo charlas divulgativas

los modos de violencia y delito que más directamente afectan a los y a las jóvenes hasta la fecha han participado

por suerte este es el marco institucional en el que nos movemos y este es el marco

contribuir pro activamente para que cualquier riesgo del uso de la violencia cuente con el cortafuego inmediato de ese objetivo de encuentro social

convivencia la paz la seguridad

escenario de actitud vigilante para no volver a situaciones del pasado que no queremos repetir creo que nadie queremos repetir es importante que toda la sociedad

pero es especialmente relevante que ningún sector político se refugie en silencios pasivos en actitudes acríticas o en posiciones

en todos estos incidentes de orden público y actos de violencia callejera ha sido constante planificada voy a decirle más y eficaz en todos los caso es más lo que la ertzaintza ha evitado que lo que ha ocurrido

siempre se logra que las consecuencias sean lo menores posibles no ha habido manifestación en la que atendiendo a la previsión de riesgos detectada por los

no se hayan planificado los operativos específicos se ha identificado imputado a personas que han participado violentamente en los incidentes de orden público

procedimientos administrativos sancionadores se ha investigado

uno a uno seguimos y seguiremos recabando información para que nuestra capacidad preventiva sea aún mayor es cierto

llegamos con la suficiente antelación preventiva pero nunca dejamos de atender como no puede ser de otra manera las necesidades que nos plantean no siempre la ertzaintza y el departamento de seguridad consigue evitar todo

las instituciones los colectivos sociales las empresas los trabajadores los universitarios y universitarias toda la sociedad vasca cuenta

para su seguridad y esta es la colaboración que junto al rechazo total al rechazo unánime de la sociedad

hará que cada vez también la ertzaintza sea más

y sigamos con el apoyo y desde luego la contribución de todos y todas sigamos viviendo en una sociedad cada día más segura eskerrik asko

artean le decía que

han sucedido diferentes hechos o acontecimientos según los calibre cada uno o cada una

mete directamente a alemania a la canciller alemana angela merkel para que

llegar a un acuerdo antes del final de su mandato que parece próximo

también lo incluye entre sus temas de negociación y entre sus temas de trabajo y desarrollo otro más es la entrevista que recientemente se publicó por lo menos

y como no probablemente el elemento más destacado de toda esta treceava ronda de negociaciones

al argumento manido también expresado por ustedes desde su gobierno

lo que iba a crear el ttip en el estado español no hace falta ser ningún

en cinco años no da para mucho si además eso luego lo dividimos en el conjunto del territorio del estado español luego lo que a la comunidad

no estaría ni siquiera muy por encima de lo que pueden ser los propios niveles de crecimiento de empleo que ustedes vienen

pero es que además de todo ese estudio estaba sostenido y no lo digo con demérito de la persona pero estaba sostenido por el estudio de una investigadora de la universidad complutense esa era toda

veracidad yo creo que hay diferentes estudios que avalan lo contrario pero como le decía lo dejo ahí porque tiempo tendré con el señor toña en todo caso de profundizar en eso

la impresión la opinión que le merece a este gobierno lo que ha parecido ya en los papeles de filtrados o dados a conocer a la luz pública

poder contrastarla como seguramente hemos podido hacer nosotros y nosotras que va a generar defendiendo un augurio de impacto positivo para la economía vasca si se aplica el ttip en los términos en los que se está negociando y acordando

un acuerdo como el ttip pero que en el suyo y así lo ha dicho también y no tengo por qué dudar de su sinceridad

usted cree que ese nivel de acuerdo alcanzado

ni impresiones de los diferentes partes negociadoras es

ha intentado trasladar aquí de manera constante tanta como la mía probablemente ante este tema esa es la interrogante principal

no nos hace sino reafirmarnos en estas tesis probablemente durante todo este tiempo se ha podido decir de nosotros y de nosotras que jugábamos al discurso alarmista

para así atraer a sectores sociales hacia nuestras posiciones y lo que se ha demostrado es que la información que teníamos la que conseguíamos obtener de una manera un poco extraña es decir a través de las filtraciones que iban sucediéndose en diferentes páginas

era cierta y lo que estábamos señalando sobre peligros sobre riesgos sobre amenazas existían y que lo que no vemos

que ustedes han venido defendiendo como contrapeso argumental a lo que nosotros señalábamos

sobre la garantía del control democrático de este tratado usted lo señalaba en su interpelación a mi respuesta decía que no cabía duda de que existía control democrático en ese tratado sigue sosteniendo realmente que hay un control democrático cuando nos hemos tenido que enterar a través de unas filtraciones cuando ha provocado reacciones de gobierno como el francés que ha dicho que en esas condiciones no lo firma y si dice eso es porque antes no lo conocía

sigue sosteniendo que es un control democrático el que existe más allá de entrar al debate este fácil de si las tres horas en el cuarto cerrado y demás cuando lo que anuncian

sin preocuparse y sin dedicar ni un solo minuto a decir si eso es cierto o no es cierto probablemente porque no pueden negar que es cierto yo creo que el control democrático

muy preservado muy respetado en esas negociaciones son doscientos cincuenta páginas se habla de textos consolidados es cierto que también señala divergencias y señala posiciones de confrontación o de conflicto entre ambas partes no lo niego pero también es cierto que en muchas de las diferencias y en muchas de las salvaguardas que establece cada parte también se señala

del área al que afecta por ejemplo y para que la gente entienda

hablo de fracking aquí vienen tres extractos reales literales de lo que dicen los papeles del ttip en ellos dice que tanto con la energía nuclear como con la energía extractiva a través del gas natural

se va a establecer un área de salvaguarda para que no se pueda meter dentro del acuerdo pero también dice justo debajo esta salvaguarda podrá ser borrada si existe un compromiso común en torno a la energía y eso no deja de ser una amenaza no deja de ser una amenaza velada si quieren pero una amenaza también hemos conocido algo que también señalábamos

en la comunidad autónoma vasca a través de una ronda de contactos de información de contraste con la sociedad civil y era que ese acuerdo estaba siendo negociado fomentado y fortalecido principalmente y casi directamente por las multinacionales el ochenta y ocho por ciento de las reuniones

un nueve por ciento con entidades de la sociedad civil pero qué revelan los papeles

una que el famoso tribunal isds el tribunal de controversias de estado inversor lo que se parece al ciadi

sin jueces de carrera y con profesionales provenientes del ámbito privado por tanto ajeno a la soberanía

a los estados si quieren preservar espacios de su convivencia o espacios de su vida en términos sociosanitarios en términos de educación y demás

realizaba una declaración que pretendía fuera importante y probablemente lo sea decía que

en la cumbre de parís los que tenían que ver con no elevar la temperatura del planeta por encima de un

de temperatura cómo se puede hacer eso compatible con lo que aparece en el acuerdo

esa normativa y que no la van a tener en cuenta cuando de manera evidente dicen que

aceptar como parte obligatoria de lo que tiene que ser el desarrollo del comercio el desarrollo del mercado cómo se puede hacer compatible esa declaración solemne con un apoyo acrítico o con un apoyo crítico al ttip que dice que no lo va a hacer plantea también la legalización de transgénicos

que tiene mucha miga pero igual lo dejo para otro momento que es el de los disruptores endocrinos y digo tiene mucha miga porque tiene que ver con las alteraciones hormonales y tiene

más porque ahí la testosterona brilla más en los debates que probablemente el raciocinio pero si acaso ya

pone que aumentarán los vertidos a aire y mar con lo cual volveremos a incumplir lo del tema del cambio climático y se señala que las condiciones laborales serán peores eskerrik asko matute jauna

bien organizado donde evidentemente todas las garantías europeas se mantengan

eso será bueno para la innovación la internacionalización de nuestras pequeñas y medianas empresas y eso lo sigo sosteniendo un acuerdo bien negociado puede suponer

en general un buen acuerdo y una buena forma de llegar a estados unidos

es verdad que nos han alertado de los problemas que pueden darse con un mal acuerdo con no respetar todas las condiciones laborales con no respetar condiciones medioambientales y muchas otras cosas es cierto

no solo organizaciones de todo tipo medioambientales o no también las propias pymes señalando qué partes pueden ser buenas qué

pero a qué problema se pueden hacer frente en este caso si estados unidos y europa logran un buen acuerdo de que se acabe el mandato obama evidentemente eso será bueno si se logra un buen acuerdo y bien organizado sabiendo que esas garantías democráticas a las que usted hacía referencia yo creo que las tenemos perfectamente garantizadas puesto que

tiene que revalidarlo en principio ante un buen acuerdo y bien negociado eso es evidente y eso es lo que dijo el propio parlamento europeo y eso es lo que hemos mantenido nosotros siempre

pero evidentemente ni de cualquier manera ni a cualquier precio en eso comparto su posición absolutamente no cediendo en aquellos aspectos que forman parte

y con unos parámetros de calidad como hemos mantenido hasta ahora y mejorándolos a futuro y no tenga usted ninguna duda que eso que decía la señora oregi evidentemente lo vamos a cuidar y lo vamos a mantener hay un aspecto que es interesante también

lo que queda fuera del acuerdo cada estado mantiene sus formas sus parlamentos sus establecimientos legales sus regulaciones lo que queda fuera del acuerdo

lo leeremos con detalle evidentemente creo que es de la máxima importancia insisto señalar lo que dijo el parlamento europeo en julio de dos mil quince y lo que establece como líneas rojas

son mantener los estándares de protección ambiental social y de seguridad alimentaria a las que están obligadas las producciones europeas

proteger las inversiones europeas en estados unidos y acabar con las diferencias de trato que existen eliminar trabas de acceso energético a productos en estados unidos

sensibles a posibles importaciones masivas mantener los estándares europeos en protección de datos para que se avance en materias especialmente sensibles en lo que hace referencia al comercio electrónico apertura de mercados estadounidenses

de transporte a contratistas europeos la apertura del mercado de contratación pública y señalan concretamente construcción

excluir radicalmente del acuerdo servicios públicos y lo dice así radicalmente como el suministro del agua salud servicios sociales sistemas de seguridad social y educación

a cómo se establecen las garantías sociales laborales y demás qué es el documento ante eso nosotros décimos

estas son las líneas rojas que nosotros hemos avalado en el parlamento europeo y estas son nuestras líneas rojas el documento que se filtra en estos momentos

es un documento realmente interesante por qué para saber cuáles son los intereses que está defendiendo estados unidos

y son evidentemente contrapuestos absolutamente contrarios a lo que defiende la unión europea y en el propio documento además se ve que son documentos que analizan

pero a nuestro juicio yo creo que son todavía documentos iniciales de negociación no son documentos finales los acuerdos que tenemos en este momento

en los documentos que existen en la propia unión europea

creo que deberían estar colgados en esa página web y que los deberíamos conocer y no solo los acuerdos finales en eso estoy de acuerdo existen sobre veinticinco o treinta capítulos que tendrá definitivamente el acuerdo acuerdo en diecisiete

como gobierno y como representante en este caso que estoy hablando por una parte estados unidos está diciendo que

no respeta nuestras denominaciones de origen no las ve en cuanto a productos alimentarios y hay tres temas que desde luego me preocupan

sectores químicos entiendo que la energía está dentro de todo eso y sectores sanitarios y realmente es preocupante la postura que todavía está manteniendo estados unidos a este respecto

de elementos que como unión europea desde luego nosotros como gobierno y en nuestra representación en la unión europea creo que tenemos que trabajar porque se mantengan en los términos en los que estaban fijados

buscando el acuerdo manteniendo esa actitud siempre vamos a intentar dar un voto de confianza a que se siga negociando en esos términos no en otros e insisto la postura de estados unidos en estos momentos está siendo todavía

y me preocupan esos aspectos pero vamos a dar un voto de confianza a que todavía todos esos elementos sobre los que no hay un acuerdo se observen y sobre todo tratando de que existan mucha más transparencia y que se vean todas esas posiciones iniciales

muy interesadas en el tratado que las conocen de una u otra forma pero el conjunto de la ciudadanía no y es cierto que yo creo que todas esas posturas iniciales debían ser conocidas eskerrik asko

las condiciones que usted ha dicho aquí pueden parecer más o menos exigentes pero desde luego marcan otro tipo de negociación

y hasta cierto punto estéril y baldío para esta cámara y para la sociedad vasca porque usted está planteando

usted señalaba que es muy democrático porque va a tener que pasar por la comisión europea o por el parlamento europeo y luego por los parlamentos

y usted debería saberlo porque si tiene la configuración de tratado mixto no necesitaría si quiera pasar por ese precepto porque se entendería que habiendo pasado inicialmente no debería pasar finalmente y eso es un riesgo que todavía

pero en cualquier caso es evidente que todavía la unión europea no ha definido lo que va a hacer con ello

claro es que lo que queda fuera del acuerdo tendrá que saber qué establece por ejemplo con una cláusula muy evidente en lo que tiene que ver con la cooperación regulatoria es decir aquello que queda fuera del acuerdo porque cada estado se lo preserva para sí lo que establece es que si cambia la ley esta ley

se les dará a las empresas un tiempo de adaptación para que puedan cumplir la ley pero en caso contrario si el cambio de la ley favorece aún más los intereses de las trasnacionales se aplicará de forma inmediata

dígame si eso no es poner a la ciudadanía y a la soberanía de los estados y de los pueblos al píe de los mercados pero también se olvida de la cláusula trinquete porque la cláusula trinquete lo que también establece

el acuerdo no puede haber variaciones por tanto si este estado si esta comunidad autónoma ahora ojala algún día un estado decidiera que quiere remunicipalizar por ejemplo o que quiere republificar servicios que antaño fueron públicos y después no lo han sido léase por ejemplo las lavanderías de los hospitales o cualquier otro ejemplo que nos venga a la cabeza no podría con este acuerdo no podría con este acuerdo y eso hay que decírselo a la gente

planteándose remunicipalizaciones de los servicios de recogida de basuras o de otras cosas

y esto también lo sabe usted pero luego hay otro elemento porque claro me habla de los serviciospúblicos para decirme que no están en riesgo

dígame que lo que no aparece de servicios públicos aquí en el ttip

y el tisa está pasando de manera más sigilosa probablemente algo de error tengamos nosotros y nosotras que estamos centrando quizás toda nuestro línea de ataque

toda la cobertura de las transnacionales para penetrar en los servicios públicos y en la prestación de los servicios públicos en la salud y en la educación de las personas

yo no tengo ningún problema con estados unidos así a priori este es un debate entre las transnacionales

y la población civil y la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas del conjunto de estados unidos de norteamérica y la unión europea que van a ser los principales paganos de las políticas que quieren llevar a efecto porque usted ha hablado de las denominaciones de origen y es cierto es una preocupación evidente pero tendría que serlo más porque la posición que están manteniendo las transnacionales es no respetar si quiera los acuerdos europeos

la denominación de origen rioja estuviera protegida y salvaguardada de

semidenominaciones que hacen con otras realidades pero hay

a una legislación norteamericana que permite desde el año mil novecientos treinta aproximadamente que las empresas norteamericanas tengan prioridad en la adjudicación de obra pública a mí eso no me parece mal yo no quiero que estados unidos quite eso lo que quiero es que ustedes lo hicieran aquí por eso nosotros planteamos el debate de las clausulas sociales por eso nosotros hemos planteado de manera reiterada y por eso le decía que estos debates afectan a muchos debates que se tienen aquí

para con sus sectores y yo no quiero que estados unidos quite esa línea de intervención o de protección para sus empresas lo que quiero es que la unión europea los tengan para ellos y para ellas y que los vascos y las vascas también los tengamos

se establece una laxitud mayor bancaria parece que los panama papers nos han desagradado a muchos pero esos muchos pintamos muy poco y a los que realmente pintan les gustaría tener más papeles de panamá y más cuentas en panamá se hablaba también del principio de salud y termino con esto

otra vez se vuelve a imponer la lógica de que se elimine el principio de precaución eso es una bomba atómica contra la salud de los ciudadanos y ciudadanas europeas porque se va a poder experimentar con sus cuerpos y con sus vidas por qué

pueda ser explotado con normalidad y sin embargo ellos sí pueden inundarnos con normalidad con productos que no están testados científicamente
sobre su inocuidad para la salud de las personas es un golpe de estado a la democracia y es un golpe de estado a la soberanía eskerrik asko matute jauna tapia anderea zurea da hitza

señor matute las líneas rojas de las que le hablaba no son desiderátum de esta consejera y de este gobierno si quiera son las líneas rojas que establece el parlamento europeo y las escribe y se las pasa

que se llegue al acuerdo pase por el parlamento y por todos y creo que lo he dicho y si no lo rectifico

los estados miembros por todos los parlamentos de los estados miembros es verdad que como esta cámara no es parte no es un estado miembro evidentemente pasará

yo no creo que haya ningún estado miembro en estos momentos dispuesto a que esas exigencias de parte de estados unidos

yo creo que usted está en estos momentos sí alertando de cosas que están escritas ahí pero que no son lo que la unión europea está en estos momentos

sino que son elementos que estados unidos está exigiendo y es evidente que en un acuerdo cada uno pone sus máximas exigencias que no nos gustan y que no vamos a aceptar

pero que la unión europea no podrá aceptarlas si de acuerdo

porque todo el tema de educación sanidad y servicios públicos en general

y usted está hablando del ttip y del tisa sí es cierto sí es cierto que estamos centrándonos en uno y no estamos abordando el otro pero sin embargo sí me gustaría hacer referencia

qué es un servicio público y qué no lo es y un servicio público es algo por lo cual un determinado gobierno paga y garantiza a su ciudadanía y otra cosa es quién lo presta en un determinado momento

garantiza que es público lo garantiza en unos determinados parámetros de calidad y lo abona y en algunas ocasiones

ciertas líneas de transporte que tenemos y en otras ocasiones será prestado por un público pero la garantía de servicio público lo da la institución y yo creo que eso es lo que tenemos que preservar en ese caso también usted está hablando de que

entre empresas multinacionales entiendo y la sociedad yo creo que nos tenemos que quedar y si es cierto que las multinacionales y los lobbies están haciendo muchísima presión por parte de estados unidos

una presión de otras características que no estemos viendo tampoco en estos momentos y lo que tenemos que conseguir es que por encima

de todos los países en este caso de la unión europea que son los que queremos garantizar el tema del intervencionismo proteccionista en un determinado momento sí es cierto que tenemos en muchas ocasiones mucha envidia de cómo se protege estados unidos y yo se lo reconozco y estamos trabajando un tema concreto que antes

y cuando estamos hablando de qué ocurre con el acero en europa nos gustaría ser tan proteccionistas como estados unidos para poder garantizar que nuestras empresas tienen unas garantías diferentes

por tanto no se lo niego me gustaría a mí también poder establecer ese tipo

más de acuerdo con lo que puede hacer estados unidos pero vamos insisto a dar una oportunidad a que se negocie el tratado de acuerdo
con esas líneas rojas establecidas por el parlamento europeo que son las que desde luego como gobierno suscribimos cien por ciento eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

esta mañana le toca a usted purgar una penitencia que no le corresponde y

en cuentos anteriores es verdad que nosotros también hemos acudido al argumento del episodio de aquel desliz verbal del viceconsejero no nos queremos detener en eso

su dimensión ya la dio el eco informativo el eco mediático y no hay más que decir pero es verdad que esas manifestaciones reflejan y delatan el subconsciente que el propio gobierno tiene en esa materia porque además

en realidad no se dijo nada que usted no haya manifestado de una manera abierta y pública cuando ha reconocido con franqueza y con sinceridad las limitaciones que hay en el servicio

a cuestiones planteadas en estos mismos términos ha apelado usted

y entonces he decidido cambiar el modo de intervención o el planteamiento que tenía de intervención

lo cierto es que al margen del episodio en concreto plantear y cuestionar lo que está siendo lanbide y el servicio público de empleo y todo lo que

sigue siendo una materia siempre de actualidad siempre de permanente control y siempre de necesario debate por lo tanto aunque no hubiera ocurrido un suceso de este tipo que nosotros lo utilizamos como argumento para traer de nuevo el tema siempre sería pertinente y procedente

entonces acudiendo al plan estratégico de lanbide de dos mil trece dos mil dieciséis empezamos con los principios rectores de lanbide

en sus servicios bueno nosotros creemos que verdaderamente

luego lo diremos pero también en materia de orientación también ha habido

en materia de formación creemos que falta relación con las empresas al objeto de conseguir formación con compromiso de contratación

otro de los principios rectores habla del diálogo permanente con los agentes sociales bueno luego tengo una pregunta que viene sobre esto también

yo he sido particularmente pesado con el tema de la mesa de diálogo social

entiendo los problemas que ha tenido el gobierno con determinadas partes del mundo sindical pero con aquellos que se hayan aprestado a digamos a formar parte de esa mesa de diálogo social ya vemos que también hay importantes

de ejecutar los acuerdos de esa mesa de diálogo social después

la cuarenta y seis hablaban entonces como una cuestión que también hemos traído aquí en algún otro momento y era la ley de empleo bueno la ley de empleo cayó y por lo tanto actividad que no va a desplegar lanbide y por supuesto tampoco su desarrollo reglamentario

en la página cuarenta y ocho línea de acción claro porque luego todo esto también hace falta algún descodificador

sí puedo ver el anunciado elaborar y facilitar información de coyuntura prospectiva útil en clave de servicio usuario final del observatorio de mercado de trabajo

que lo que se ha planteado en esta estrategia no concuerda con las dificultades de comunicación que se están dando con las entidades colaboradoras en bastantes casos

oficinas comarcales y lo que nos comunican es que muchas convocatorias se están retrasando quedan digamos remansadas en la oficina de control económico como

salen cuando salen o no terminan de salir página cincuenta

verá nosotros creemos que realmente

la parte más importante o el desafío más importante del servicio público de empleo porque aquí en estos días sobre todo ha cobrado

la intermediación que plantea lanbide si es mucha si es poca si está por encima del resto claro la intermediación tiene que ver en todo caso con personas que ya tienen alguna empleabilidad sin embargo

las que tienen mayores dificultades de inserción para eso la orientación es importantísima los itinerarios de inserción personalizados son fundamentales y aquí ahora ha cobrado como digo mucha importancia el debate sobre la intermediación pero creemos que hay que poner el acento sobre todo en la orientación y como veo que se me está pasando el tiempo que no pensaba

sistema de reconocimiento de certificaciones de los certificados de experiencia profesional bueno aquí hemos tenido también algunas cuantas quejas porque

la expedición del certificado exige y esto también ha dado lugar a quejas de los sectores concernidos en concreto aquí vinieron con bastante preocupación por ejemplo las empleadas las que

aquello cayó en el primer cuarto de hora antes de que se publicara el propio

y luego por último pues en fin el lehendakari también planteaba y cuestionaba quién ha de gestionar las ayudas sociales las prestaciones sociales que las lleva lanbide

qué opinión tienen de todo esto porque en su momento cuando se decidió vincular las políticas activas a las pasivas precisamente era para tratar de mejorar la empleabilidad creemos que en fin con todas las dificultades que supone y

se ha prodigado sus mayoresesfuerzos en la prestación de la rgi y pensión complementaria de vivienda

comprende acepta y entiende que es importante que las políticas activas de empleo estén vinculadas a las políticas pasivas y por lo tanto tengo que llevar a cabo la pregunta ritual cuáles son las intenciones del gobierno vasco

bueno los datos que ha dado con anterioridad a los otros parlamentarios

yo ya contaba también con que el gobierno vendría siempre cargado de datos su quehacer que todo no será por ejemplo para que vea que todo no es crítica

también podemos apreciar que en algunas áreas se mejora pero señor consejero el origen de esta interpelación como digo no es

pero sí constata que el propio gobierno y usted en fin en algunas manifestaciones ha reconocido

qué van a hacer en lo que queda de legislatura para superar esos déficits y esas debilidades eskerrik asko itxaso jauna erantzuteko toña jauna zurea da hitza

primero agradezco el tono de su intervención señor itxaso se lo agradezco de verdad

ez zait gustatzen asko permítame que haga un poco de repaso a lo que ha sido esta legislatura trataré

será inevitable en cualquier caso sí le quiero decir una cosa si las palabras del viceconsejero se correspondían con un inconsciente

el subconsciente en todo caso quizás corresponda más a la ciudadanía

también el gobierno es parte de la ciudadanía en enero de dos mil trece a la llegada de este nuevo ejecutivo después de la legislatura anterior la mejora en la tramitación de algunos asuntos ciertamente el de los colectivos más vulnerables

ha sido un objetivo prioritario y así esto no son datos repetidos se han eliminado las colas estructurales de las oficinas aquellas fotos que veíamos

y también se han incluido el cumplimiento de los mandatos de esta cámara una y otra vez se han reducido los días de demora en la tramitación de los expedientes

a los cuarenta y seis días actuales estamos dentro de los sesenta días se han mejorado sustancialmente la calidad de la resolución de los expedientes como lo demuestra la bajada de un cuarenta y dos por ciento del número de recursos de reposición interpuestos entre dos mil trece y dos mil catorce o las quejas del ararteko que han disminuido a la mitad

hemos mejorado y le agradezco su reconocimiento los procedimientos contra el fraude y el no cumplimiento de los deberes como perceptores de mil trescientos suspensiones al mes y se han perseguido en colaboración con la ertzaintza las organizaciones promotoras del fraude en las prestaciones

que estamos en un proceso de reflexión profunda sobre aspectos a mejorar en la gestión de la rgi que esperamos poder trasladar a esta cámara en breve y otro dato durante el año dos mil doce se tramitaron cuarenta y cinco mil expedientes de rgi

se ha multiplicado por cuatro y encima lo resolvemos en plazo

de estas tramitaciones treinta y tres mil han sido revisiones en total

de todo lo que se tramita se está controlando más y mejor se revisan más expedientes

y eso hace que afloren más reajustes de nómina que a veces sufrimos críticas por ello pero tengo que matizar que esta prestación es una prestación viva y absolutamente necesaria para los que la piden y por lo tanto

el día uno de cada mes y hace y hará que se sigan generando estos reajustes de nómina necesariamente pero

cero por ciento sabe cuánto se ha reclamado en dos mil quince cien por ciento

y no me importa por supuesto compararme con españa pero sí me va a permitir que me compare con el de europa ya que podemos hacerlo a través de los indicadores arope que son conocidos por todos ustedes

con una de las tasas más bajas de europa el gobierno este departamento y lanbide trabajamos para que las personas

aquellas personas que estén capacitadas para ello y es por eso que se han dado

de intervención integral en personas y en empresas con el fin de desplazar el enfoque actual de intervención centrado en servicios hacia resultados e impactos en las propias personas que usted me lo ha pedido también se lo indicaba anteriormente a la señora garrido

pero los frutos están también aquí el número de diagnósticos personalizados me lo ha recordado

se han incrementado en un ciento ochenta por ciento desde el dos mil trece el número de itinerarios personalizados se ha incrementado en casi un setenta por ciento

autocomplaciente y el día que lo sea entenderé que sean ustedes muy críticos con nosotros

señor itxaso esta no es autocomplacencia son datos y son datos reconocidos con contextos

y gracias a los pasos dados a los avances realizados a día de hoy podemos decir que el sistema con sus dificultades protege a nuestra población más vulnerable favorece la inclusión de los colectivos más desfavorecidos a los que usted hace referencia y que a mí a veces me provocan cierto sosiego porque yo a veces suelo tener la impresión de que

a los colectivos más desfavorecidos y se nos ataca precisamente con criterio a veces que no atendemos suficientemente a los colectivos de mayor empleabilidad

y activamos laboralmente a las personas en euskadi seguiremos activando más y dejo para la segunda parte algunas de las otras consideraciones que

que usted mismo se ha dirigido a mí eskerrik asko toña jauna itxaso jauna zurea da hitza

hombre es importante ser moderado en las formas y radical en los contenidos

y sobre todo porque uno no tiene más razón porque su rictus su gesto sea más

claro yo acepto todo lo que usted ha dicho tanto en respuesta a este parlamentario como a los que me han precedido sobre esta temática lo acepto pero entonces a mí me surge una duda importante y es cómo con todas esas mejoras evidentes el prestigio del servicio público de empleo es el que es

la opinión que del mismo tiene ha sido motivo de

y me sorprende mucho porque el gobierno y el partido que le sustenta si algo hace bien es precisamente la propaganda y

vender con bastante solvencia lo que hace o incluso hasta lo que no hace entonces cómo es posible que el servicio público de empleo

y pese que a esas mejoras continúas que el gobierno va haciendo que yo las doy por supuestas y las acepto pero no se corresponde con

entidades colaboradoras sindicatos grupos de la oposición hombre es demasiada coincidencia demasiada unanimidad

de lanbide del servicio público de empleo por eso

sin dudar de que esas mejoras concretas la reducción de colas en fin la

si hay que felicitar se felicita entiendo que es tarea natural del gobierno pero cómo es posible que pese a todo

ese prestigio vaya en retroceso si es que cabe más retroceso pero no mejora opinión del servicio vasco de empleo luego dice que cumplen con los mandatos hombre yo me suelo encebollar con algunas cuestiones que

voy con ellas entonces vuelvo a sacar centros especiales de empleo que

como una monserga pero es que afecta a personas especialmente vulnerables como son las personas con algún tipo

y entonces claro yo estoy sorprendidísimo de que el observatorio vasco de economía social que ayer tratábamos sobre este tema

pero si no se ha creado el registro y sin ese registro no se puede habilitar empresas es una pregunta que le formularé no sé en qué medio pero es que me crea

acuerdo que aquí se ha tomado en varias ocasiones el gobierno sigue sin cumplir y mandó un borrador de decreto que en fin a la luz del derecho autonómico comparado

fin ahora no lo recuerdo pero le podía haber incluido otras cosas que en otros decretos de

que no se cumple entidades colaboradoras en fin tanto las públicas como las privadas

y claro las entidades públicas mayormente son agencias de desarrollo es decir que son negociados municipales mancomunados eso entronca precisamente con lo que es otras de las determinaciones del plan estratégico en fin estar en conexión con las necesidades comarcales y locales

no sé si ruptura de comunicaciones pero desde luego alguna dificultad manifestada por estas entidades

lo que le pregunto es con todos esos esfuerzos que ustedes hacen para mejorar que indudablemente algunos resultados dan la opinión de los usuarios de los partidos de los sindicatos

satisfactoria y por eso preguntamos qué van a hacer ustedes más allá de estas mejoras concretas para lograr
que sea un servicio público de referencia como debe de ser lanbide nada más eskerrik asko itxaso jauna toña jauna zurea da hitza

donde tenía apuntado empezar recordando la responsabilidad en qué situación recibimos lanbide en dos mil doce al menos lo cito la opinión y el del servicio de las oficinas de empleo es una cuestión no vasca

yo no sé si usted se acuerda pero yo no sabía el nombre de las oficinas de empleo porque siempre me salía la palabra oficinas de desempleo porque

la opinión pública solo las entendía para apuntarse para el paro

claro cambiar una opinión una cultura

de una organización de un servicio es algo que lleva un tiempo yo creo que todos y en esto

creemos en el servicio público de empleo vasco y creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo unánime además en tratar de ir cambiando poco a poco

que comparto evidentemente con usted pero que desde luego no es la de lanbide sino la de los servicios públicos de empleo en españa qué mal se habrá hecho en la historia para que tengamos que pesar tanto tiempo con esta losa y con eso no soy autocomplaciente

que lo recoge un informe de conclusiones y recomendaciones de la evaluación de los factores que inciden en el desempeño de lanbide texto literal de un doc documento que se nos entregó en la conferencia sectorial de empleo

por el ministerio de empleo y seguridad social en madrid pues bien le voy a citar algunas conclusiones

durante su corta andadura ha asumido un reto que ha supuesto la fusión de tres estructuras como bien sabemos con la consiguiente reordenación organizativa y de gestión

la gestión de la renta de garantía de ingresos cuestión que se debatió ampliamente antes la prestación complementaria de vivienda antes gestionada por las diputaciones y por lo tanto ha tenido que desarrollar servicios no obstante dice lanbide

de procesos como demuestra el hecho de que en su plan estratégico se definan líneas de actuación específicas orientadas

lo dice una auditoría encargada por el ministerio de empleo la deloitte y en la que

con algunos sobresalientes muchos aprobados y algunos suspensos pero que la mayoría de los servicios públicos de empleo españoles aparecen con casi todo suspendido

seguir trabajando como no puede ser de otra manera en posicionar a lanbide como referente ante las empresas este informe si ha servido para evaluar los servicios de empleo estatales podemos afirmar que lanbide y su labor como servicio vasco de empleo están entre los mejores de españa y repito

agradezco que usted no me haya caído otra vez en el recurso del error le agradezco sinceramente creo que todos tenemos que trabajar por un sistema que proteja

de los trabajadores y que active laboralmente a las personas en euskadi un sistema en el que ustedes

tratamos de mejorar y que espero la siguiente legislatura lo mejore aún más acepto su crítica con respecto a la cuestión del registro de centros de inserción

el apoyo unánime necesita perdón el apoyo unánime de todos y todas los parlamentarios de esta cámara sin excepción

pido apoyo para garantizar un servició público que trabaja a favor de los ciudadanos vascos y sobre todo de aquellos que más lo necesitan

argitu beharrekoa da berriro eta berriro argituko dut no es nueva la aclaración que hago pero como usted reitera las mismas cosas que dice siempre tengo que reiterar qué significa una subvención a fondo perdido por investigación y ocurre como ocurre en toda europa y en todo el mundo

en el único momento en el que existe un fallo de mercado qué es ese momento cuando la iniciativa privada no llega porque no tiene capacidad o

única y exclusivamente en ese momento cuando tiene sentido y se puede intervenir públicamente con subvenciones a fondo perdido porque el proyecto lleva riesgo y eso
son las ayudas que tenían los proyectos hiriko y epsilon ninguna otra cosa eskerrik asko tapia andrea

egun on ya siento parecerle tan pesado o ser tan pesado la pregunta no era en relación a si este proyecto o qué tipo de proyecto era

algo en relación a los planteamientos o a las consideraciones que se le habían pedido al gobierno a través de la comisión

y hay que recordar porque habría que ponerse también

hace ya unos meses aparecían noticias de los diferentes tribunales de cuentas refiriéndose al caso de epsilon e hiriko diferentes noticias y ninguna de ellas buenas al menos por lo menos desde nuestro punto de vista en relación a lo que era un proyecto que por muy de investigación que fuese por lo menos se le debería de exigir unos mínimos y el mínimo

que la gestión de dichos proyectos fuese decente y no lo fue en ninguno de los casos y es que estamos viendo cómo los responsables tanto de epsilon como de hiriko el de epsilon ya no está está inhabilitado en su gestión

los de hiriko ahora también se enfrentan a lo mismo

de epsilon está en un proceso penal también y los de hiriko seguramente

cómo nos puede usted decir que la gestión y que el proyecto de investigación ustedes lo dan por bueno cuando no hay absolutamente

y cuando los tribunales están diciendo que la gestión de dichos proyectos fue más allá que inadecuada incluso tienen algunos cargos de los que se les imputan de tipo penal no puede ser bueno es decir ustedes se pueden poner todas las vendas en los ojos

que eran los que denunciábamos nosotros y nosotras el parlamento a través del dictamen le hizo unas recomendaciones

qué se ha hecho para que no vuelva a suceder y las recomendaciones eran muy claras se hablaba de reforzar con procedimientos de mejora

de actividad y objeto social de la red de parques tecnológicos se hablaba también de instar al gobierno

porque el error del gobierno en ese momento fue clarísimo y no solo en el dictamen aparece sino que también

que más allá de que pueda ser un proyecto exitoso en lo que se refiere a la investigación

la gestión fue catastrófica pero no solo eso es que nos está costando dinero

usted diciéndonos hay por lo menos dos ofertas puestas encima de la mesa y seguro que una sale y no solo eso vamos a ganar dinero no vamos a cascar dieciséis millónes sino que vamos a ganar veintiuno qué ha pasado

un éxito rotundo con este gobierno es un éxito rotundo

es que dichas ofertas están decayendo siempre cuánto nos cuesta mantener ese pabellón no hay una responsabilidad política de haber comprado ese pabellón a través de una cesión hipotecaria qué pasa aquí

impedir que situaciones como estas vuelvan a ocurrir o seguimos dando el dinero a los amiguetes del partido

simplemente siento que estamos debatiendo siempre sobre las mismas cosas

y lo que he pretendido decirle es una cosa es un proyecto de investigación que conlleva un riesgo muy importante siempre y sino pregúntelo y una cosa es lo que usted piense o lo que yo pueda pensar y otra cosa son las realidades un proyecto de investigación siempre

otro aspecto es la gestión de un determinado proyecto y en este caso estamos hablando de dos proyectos que realmente no han tenido una gestión ejemplar y se está dirimiendo

y en tercer lugar estamos hablando de qué he hecho yo qué ha hecho este departamento con las sugerencias que se hicieron que tampoco me lo ha preguntado usted así pero bueno le voy a responder qué medidas he adoptado

en primer lugar usted me habla de la pérdida de dieciséis millónes de euros no se ha perdido los bienes están ahí es cierto que no hemos tenido éxito en poderlos vender es cierto pero están ahí no se han perdido están ahí no han desaparecido no se han volatilizado en el aire la infraestructura existe en segundo lugar en lo que hace referencia

que es donde realmente había más cosas que hacer bien se ha reforzado con personas se ha reforzado con una labor de monitorización y seguimiento mucho mayor

que permite evaluar el proyecto cuando se presenta

año a año de ese proyecto monitorizarlo y además evaluar los resultados

por tanto un sistema de monitorización y evaluación que no existía en tercer lugar se ha modificado todo lo que es la red vasca de ciencia tecnología e innovación como usted sabe para mejorar el proceso de evaluación de su cumplimiento y de cómo

y en último lugar se ha modificado además los programas de subvenciones dedicados a la red vasca de ciencia tecnología en su conjunto a las empresas en particular de tal forma que nos permite mejorar la intensidad y poner más intensidad en esa evaluación y mejorar los resultados que estamos obteniendo
todas esas recomendaciones están ya implementadas para mejorar la seguridad y el seguimiento de esos proyectos eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea gai zerrendako hamabosgarren puntua galdera

laboral la pregunta que viene a continuación tiene que ver con el levantamiento de la mesa de diálogo social de comisiones obreras por entender que se estaban retrasando en el cumplimiento de los acuerdos adoptados concretamente señalaban el contrato de relevo

veía suficiente razón para salir de la mesa

hombre los retrasos habidos terminan por ser un poco exasperantes algunos grupos en esta cámara

sentir cierta irritación por esas porque no lo recordará quizás pero en el debate de presupuestos yo le pregunté a usted por el tema del decreto

que hablaban de que esos decretos que se habían suprimido y que se trataban de

con una resolución era suficiente que no harían falta decretos para entonces

esto es lo que me contestó me dijo hemos llegado a la conclusión de que ni siquiera va a ser necesario afortunadamente para los jóvenes y los mayores hacer un decreto sino que bastará con una resolución del director general de lanbide para optar poner en marchar el contrato de relevo bueno sabe cuándo sacaron esa resolución se publicó el catorce de abril una vez que comisiones obreras se levantó de la mesa

qué va a hacer el gobierno qué va a hacer usted su departamento para restituir la confianza de los agentes sociales que estaban en la mesa porque es que también

ya son ganas de dar la razón a los que han cuestionada la mesa de diálogo social desde la parte sindical son ganas de darle la razón

baimenarekin eserlekutik señor itxaso los agentes sociales no han trasladado

esa pretendida pérdida de confianza ni han abandonado la utilidad de la mesa de diálogo social en consecuencia no la tienen que recuperar como usted

que a los agentes sociales no les afecte en vísperas electorales esta cuestión ya que los asuntos importantes que en estos momentos están sobre la mesa de diálogo social tienen que ver con una relación

entre trabajadores y empresarios en los que el gobierno poco tiene que decir eskerrik asko toña jauna itxaso jauna zurea da hitza

insistente en el tema de la mesa de diálogo social sobre todo en la primera parte de la legislatura

el gobierno después de haber estado gobernado los socialistas pero en este punto

de toda la legislatura este gobierno tardó dos años en entender que no había color

con la central mayoritaria y con lab dos años en los que la mesa no tuvo ningún cuando al final se deciden a hacerlo con aquellos que estaban dispuestos

y vemos que efectivamente esos acuerdos como denunciamos aquí por parte de la oposición en muchas ocasiones

y luego veo que en algunas de las manifestaciones que hace en los medios venía a decir que es que hay dificultades técnicas y jurídicas para hacer los decretos

que los servicios jurídicos nada más y nada menos que de este gobierno puedan tener dificultad para hacer decretos que en el fondo en el fondo están reproduciendo decretos anteriores y no puedo creer que cuando está elaborando un texto sobre disposiciones generales en materia de políticas activas de empleo

que es que creo que en diferentes momentos ha corregido un poco

por lo tanto a la larga lista que le he planteado antes de entidades no muy satisfechas con la labor del gobierno

eskerrik asko mahaiburu andrea con usted señor itxaso yo también quiero impulsar

pero no me voy a parar ni un minuto porque no esté alguien

para darle unos datos hemos estado trabajando junto con los miembros de la mesa de diálogo social que por otro lado tiene una foto de vez en cuando que conmigo no se ha hecho nunca porque no la quiero

pero que muchas veces lo que trabaja son en forma de comisiones técnicas bueno pues ha hecho esta reunión con la culminación de la estrategia vasca de empleo dos mil veinte

trece de abril celebramos con su participación un encuentro con más de cien personas a fin de llevar a cabo el debate y contraste de la señalada estrategia que será aprobada este mes

y otras que evidentemente tengo con otros secretarios y otras secretarias generales

el único tema que queda pendiente de aquellos acuerdos el programa de empleo en la edificación y rehabilitación sostenible

y por qué señor itxaso porque los acuerdos son acuerdos de contenidos políticos y laborales que luego tienen que pasar por filtros jurídicos y que no siempre los pasan

el dictamen desfavorable fue trasladado todavía a la mesa el pasado siete de abril a la comisión técnica planteándoles la conveniencia de mantener un encuentro

pero el asunto de mayor trascendencia en este momento es ciertamente el debate sobre el modelo de relaciones laborales y la negociación colectiva

confebask presentó su documento principios y criterios

se trataba más bien de una cuestión de gestión de los recursos humanos pero se dio por supuesto estaría bueno por bueno en la sesión del diez de febrero los sindicatos comisiones

expusieron su documento la negociación colectiva y las relaciones laborales en euskadi

que lo habían trasladado con antelación ambas partes quedaron emplazadas a negociar un planteamiento común y ante las profundas diferencias propusieron al presidente del consejo de relaciones laborales para que contactos a fin de retomar el proceso ambos planteamientos constituyen propuestas para su debate y posterior acuerdo acuerdo que corresponde adoptar a los representantes de los trabajadores y no al gobierno en función

para el correcto funcionamiento del mundo laboral el asunto es suficientemente importante y tiene alcance porque no dudo

pero todo lo expuesto no es óbice para que se puedan hacer planteamientos en la mesa de diálogo social para reformular el alcance y los ámbitos de participación de los agentes sociales a futuro

en la que más se puede hacer y mantengo nuestra apuesta para que los agentes sociales y el gobierno dialoguen y traten de acordar las cuestiones que de verdad afectan a los trabajadores vascos en esa mesa

gracias presidenta buenos días consejera buenos días señorías

en que las leyes que tienen que promover la igualdad entre mujeres y hombres hay que en que las leyes tienen que promover la igualdad entre mujeres y hombres allí donde se detectan

y en que además estamos de acuerdo en que se otorgue seguridad jurídica a la forma en la que queremos favorecer esa igualdad

un cuerpo consejera fuertemente masculinizado con una presencia mínima de agentes mujeres y sobre todo de mandos

de decirlo hasta ahí la paradoja y recordarán también que se dictó sentencia por la que se anuló la forma en que habíamos convenido desde las instituciones cómo favorecer la igualdad de oportunidades para las mujeres en la ertzaintza

correspondía ofrecer un nuevo marco normativo y sobre todo hacerlo de forma rápida

al principio del mandato puso una fecha primer trimestre del dos mil quince luego en esas propias actualizaciones que ustedes sabrán con qué criterios se han hecho porque nunca nos los han explicado lo han ido retrasando y ahora

no ha llegado esta ley a dos meses de que finalicen los trabajos en esta cámara esto es absolutamente inaudito yo le hago una pregunta pero a mí se me ocurren tres respuestas o bien todo lo que dicen recoger en la ley para tener una policía más eficaz

ni sus propios agentes así que es mucho mejor traerla cuando no hay tiempo para que se debata mucho sobre esto

de la que enarbolan ahora y que proclaman a los cuatro vientos no está entre sus urgencias o bien y simplemente es que no tienen una idea de cómo regular esto

salvaban su mandato horizontes perdidos consejera

efectivamente cuando elaboramos el calendario legislativo los primeros meses de dos mil trece

era culminar este proyecto normativo en el primer semestre de dos mil quince pero se modificaron esas previsiones para atender mejor a las propuestas recibidas y se comunicaron los nuevos plazos a tiempo ambas cosas por tanto previsión y comunicación con el calendario modificado nos comprometimos a remitir el anteproyecto al consejo de gobierno en el primer semestre de dos mil dieciséis objetivo cumplido

el consejo de gobierno aprobó el proyecto de ley nos comprometimos a aprobar cinco leyes en esta legislatura tres son ya una realidad

prevención y extinción de incendios y salvamento acabamos de retirar porque llevaba nueve meses en este parlamento sin que se debatiera y porque se ha roto el consenso con el que se elaboró

a la retirada presentando una enmienda a la totalidad ahora nos achaca que llegamos tarde con la ley de policía vasca yo creo que son excusas señora gallastegui hay tiempo no hagan lo mismo que con el proyecto de ley de prevención y extinción de incendios y salvamento

así a dar un impulso decisivo a la incorporación de las mujeres a los servicios policiales tal y como está demandando esta sociedad

le escucho consejera y llego a la conclusión exactamente igual

las razones del retraso son las tres de las que le hablaba falta de proyecto policial poca prisa con la igualdad y absoluta ausencia de feeling con quienes tienen que hacer posible la ley que por cierto son esas personas que se manifiestan

falta de respeto a esta cámara y también una quinta pura propaganda ustedes han remitido esta ley

porque llevan remitiendo en los últimos días leyes a peso

la cuestión inédita consejera de que hasta la fecha todavía no ha llegado aquí este proyecto de ley

y usted tiene pedida una solicitud de comparecencia hace ya tiempo

algo que todavía no nos ha remitido y que no conocemos y además ahora este gobierno su gobierno consejera con absoluta desfachatez pretende echar la pelota al tejado de esta cámara donde todos los grupos hemos dado muestras de una gran capacidad de trabajo y una productividad mucho más elevada que la del gobierno

para en su caso intentar justificar porque no lo va a poder hacer su inoperancia

con todos los medios a la alcance de su mano ha tardado en elaborar tres años y medio y encima usted miembro de este gobierno que acusa

a quienes nos sentamos aquí de no facilitarles esos proyectos de bajo coste que nos está remitiendo a machamartillo
en los últimos días va y pide comparecer eskerrik asko gallastegui anderea beltrán de heredia anderea zurea da hitza

voy a insistir en ello para que saque cuentas también y compare el departamento de seguridad aportó al programa legislativo de gobierno para esta legislatura cinco proyectos de ley

la ley de modificación de la ley de gestión de emergencias también la ley de espectáculos públicos y actividades recreativas también está aprobada de cinco tres

que de los seis proyectos a los que se comprometieron en la legislatura pasada siendo ustedes el partido socialista responsables políticos del departamento de interior

una solamente una nuestra cuarta ley la ley de prevención y extinción de incendios y salvamento llevaba ya más de nueve meses en el parlamento sin el más mínimo esfuerzo por debatirla y mejorarla con un cambio de criterio de ciento ochenta grados a última hora por parte de dos de los tres partidos que

tampoco tenían ninguna voluntad porque existiera ningún texto normativo ahora me dice que hace falta que no tiene tiempo pues mire tampoco lo es una excusa para que el proyecto de ley de policía que acabamos de remitir a este parlamento se pueda elaborar

de las mujeres en la policía del país vasco incorpora como le decía también la carrera profesional la regulación de la carrera profesional tan demandada por los ertzainas y también incorpora dentro de su contenido

europeo de ética de la policía por tanto creo que es una ley importante que recoge reivindicaciones que recoge normativa importante para la

que en la parte que le corresponde también den un impulso para la aprobación de esta ley eskerrik asko

señora consejera señorías buenos días de nuevo bien recientemente este parlamento aprobó

nuevas limitaciones a la venta suministro de todo tipo de bebidas alcohólicas y a día de hoy lo que pretende esta pregunta es clarificar porque hay alguna duda al

hay alguna valoración contradictoria por ello lo mejor de todo es que sea el propio consejero de salud quien diga cómo piensa aplicar la ley en relación con algunas cuestiones nosotros hemos hecho una pregunta en relación con las zonas

por qué no porque nosotros no tengamos claras algunas de las cuestiones sino porque hay un debate público en este momento y que en ese sentido es bueno ser claros y en ese sentido es bueno pedir al gobierno entendemos que diga

durante estas últimas semanas en algunos medios de comunicación diferentes actores incluso

supuestamente a través de los medios de comunicación con el departamento de salud

de los recintos deportivos de la comunidad autónoma vasca ese debate también

vuelvo a decir por lo que se lee a través de los medios de comunicación y por eso la clarificación

en sus instalaciones antes y después de que el árbitro indique el comienzo el final del partido respectivamente es decir hay un debate en relación con esta cuestión

queremos clarificar en ese sentido y al objeto de que

en relación con ese debate público que hay o vuelvo a decir también he oído de juristas

saber del alcance desde su departamento señor darpón de los preceptos existentes en la

que qué alcance tiene el precepto que prohíbe el suministro y venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas

de dichos recintos deportivos muchas gracias eskerrik asko barrio jauna darpón jauna zurea da hitza

en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas y estoy seguro que usted y yo vamos a coincidir en el criterio

que aprobó la ley y además también es miembro de la ponencia en la que el texto se debatió nuestra posición es clara el artículo treinta y uno punto tres de la ley integral de adicciones y drogodependencias de euskadi prohíbe la venta

en las instalaciones en las que se celebren competiciones deportivas

sociosanitarios y de servicios sociales la prohibición de suministro y venta de bebidas alcohólicas es igual para todos asistentes a la celebración del evento deportivo con independencia de cuál sea la ubicación de su localidad behar bezain

no cambia en función de la ubicación de la localidad eskerrik asko darpón

muchas gracias señora presidenta y gracias también al señor darpón ha sido bastante claro es decir el departamento ha comunicado ya

deportivos que tienen instalaciones deportivas con zonas vips donde hasta ahora se podía consumir alcohol algún tipo de circular la aprobación de esta ley vuelvo a decir porque hemos visto que había alguna interpretación que hablaba de

en instalaciones deportivas donde se celebran eventos deportivos lógicamente pero a partir de que el árbitro pite o no pite ha habido una especie de debate el principio del partido

es decir por ejemplo en san mames diez minutos antes de que el árbitro pite el partido

se podrá beber en las zonas vips muchas gracias eskerrik asko

bueno yo creo que la ley es clara y conocen todos ustedes el espíritu con el que se ha aprobado dado la mayoría con el que se aprobó nos hemos dirigido a los diferentes clubs deportivos

la interpretación que entendemos que da la ley horri dagokionez oso argia da nire hitzaldiaren lehen zatian

puntu hiru xedapena no obstante también hay que decir que en estos momentos en el que esta nueva ley inicia su andadura

de entrada en vigor pueda haber agentes afectados que se estén adaptando al nuevo marco normativo

pueden tener que modificar usos y costumbres arraigados en este sentido entendemos que es muy importante mantener una actitud proactiva

y veraz y en ese sentido estamos trabajando desde el departamento de salud

en las instalaciones en que se celebren competiciones deportivas es igual para todos y todas las asistentes con independencia de cuál sea su ubicación

hasta que se cierran después de la competición deportiva

que para nosotros es muy importante aunar esfuerzos instituciones públicas deportivas asociaciones y sociedad en

a favor de la prevención y en definitiva a favor de una euskadi comprometida con la salud y el bienestar y a favor de conseguir los objetivos en términos de salud que creo que están

en que esta cámara aprobó la ley dado que la prohibición de venta distribución y consumo de alcohol no es una novedad de esta ley en las instituciones deportivas sino que al menos en otros dos textos legislativos anteriores figuraba de la misma manera cuento con usted y con su grupo

aplaudimos y apoyamos que la prohibición de fumar o ingerir bebidas alcoholices en los recintos deportivos a todas las personas por igual independientemente de dónde se sienten o la localidad que ocupen se sienten en una grada u ocupen una butaca

que hasta la aprobación de esta ley eso no ocurría por tanto se termina con ciertos privilegios que no compartíamos ni compartiremos baina gaur bertan esan beharra dugu

coincido con usted esto no es cuestión de interpretaciones ni de opiniones y por lo tanto

doy por hecho que conoce usted cuál es el alcance que entendemos

y también con los cambios que se han producido en la norma y que este parlamento ha aprobado el departamento de salud del gobierno vasco considera que la prohibición de suministro y venta de bebidas alcohólicas en las instalaciones en las que celebren

no es compatible con el consumo ni antes ni después de la celebración del evento deportivo y así se ha hecho saber a los responsables de las instalaciones aludidas pero lo vuelvo a reiterar

del deporte del país vasco en su artículo ciento tres y está también en vigor

competiciones deportivas la introducción y venta de toda clase de bebidas alcohólicas ni nuestra ley del deporte del país vasco ni la estatal

establecen diferencias respecto a las diferentes zonas o localidades en las instalaciones deportivas la prohibición establecida afecta a todas y todos los asistentes a la celebración del evento de que se trate

entendemos que tampoco es un tema ni de hacer privilegios que no vamos a defender en ningún caso ni tampoco de generar problemas entendemos que el espíritu de la ley es ligar deporte a ejemplaridad ligar deporte a salud y eso vamos a defender en todo momento

sí hace un momento le decía que nosotros teníamos nuestra opinión y nuestra opinión es que

o unas pocas después de la reunión de la ponencia además nos quedó muy claro que eso era precisamente lo que estábamos aprobando porque recuerdo precisamente que pregunté de manera muy expresa en una de las reuniones de la ponencia si estábamos dejando alguna puerta abierta

creemos que se está haciendo una discriminación positiva obviando además otras realidades porque sería tremendamente grave que esa excepción

ambigús de clubes por ejemplo de municipios o en frontones estén acatando la ley y se sortee precisamente solamente para que estos señores o señoras se sienten en esos palcos a beber

después de las declaraciones que hicimos varias personas que trabajamos en esa ponencia quedó una duda porque uno de los parlamentarios que participó en esa ponencia dijo que ese artículo estaba sometido a varias interpretaciones y que habría que ver qué decretos se van publicando

la respuesta del gobierno en este caso lo que queremos en este caso ya sabemos que lo comparte es denunciar

que denunciarlo no se pueden excepcionar zonas y mucho menos para cuatro o cinco personas quizá porque piensen que igual un menú de estrellas michelín maride mejor con un rioja y el bocata de tortilla de patatas en la grada tenga que maridar con agua forzosamente o con una cerveza sin alcohol y lo que tampoco entendemos que esto vaya a crear un problema porque se supone que la gente que va a esos palcos vip va a ver un partido de fútbol

entonces porque sino algo estamos haciendo mal algo estamos haciendo mal

hay que tomarse cuatro o cinco gin tonics antes bueno

visión y nuestra interpretación lo que ahora deseamos es que además de aplicarse esa ley en ese artículo se aplique también en el régimen de inspección
y sancionador que es lo que corresponde a partir de ahora eskerrik asko eskerrik asko blanco andrea darpón jauna zurea da hitza

blanco andrea yo creo que la posición en este caso

sin embargo yo creo que hace usted mal en demonizar algún caso concreto porque en las primeras semanas de aplicación como vuelvo a repetir probablemente

más de un agente no solo profesional sino también de otras modelos no profesionales escolar juvenil etcétera que necesitan adaptación incluso por parte de instituciones

y luego yo mire como soy socio de una de ellas no me prodigo demasiado

pero no de por hecho que ustedes no aparecen por el palco eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

y la situación de las defensorías de derechos humanos que considera que todas las inversiones europeas deben formar parte de un conjunto sólido de políticas de salvaguardias ambientales y sociales

que aseguren que no se facilite ayuda europea a proyectos que no cumplan con el requisito de la consulta previa libre e informada a las comunidades indígenas garanticen una consulta significativa de todas las comunidades afectadas

lau el parlamento vasco apoya la comisión internacional formada por el comité

alto comisionado de naciones unidas para investigar el asesinato de berta

y de ese modo poder contar con verdad justicia y reparación bost eusko legebiltzarrak hondurasko gobernuari igorriko dio adierazpen instituzional hau